en el plan de salud con una vigencia dos mil trece dos mil veinte se destaca la importancia de la prevención y la promoción de la salud

y hábitos saludables en relación con la alimentación la práctica de ejercicio físico tabaco y alcohol gobernuaren akordioan

bultzatzea eta plana ere egitea la elaboración de una estrategia de alimentación saludable y la elaboración de un plan de prevención de la obesidad infantil

de las intenciones que tiene este gobierno tal y como aparecen plasmadas en el plan de gobierno

sustanciada el otro día en la respuesta que formuló a la realizada por este grupo sin embargo nosotros entendíamos que era necesario poner a dichas intenciones a dichos compromisos fechas

dichas previsiones estaban ya recogidas en el plan de salud aprobado en el año dos mil trece es cierto que tiene una vigencia de siete años

que en otras partes pero también las cifras para nada llaman al optimismo y es necesario

ámbitos como decía en el propio plan de salud se habla del

que tenga presentes las desigualdades de género y que

ha de elaborarse de forma coordinada con otras instituciones

como queda claro en el plan de salud y en los numerosos estudios que se han realizado sobre esta cuestión tanto la obesidad como el sobrepeso constituyen un problema de salud pública

de abordarse desde distintos ámbitos está relacionado con el nivel cultural con los recursos económicos condiciones de vida entorno familiar y lugar en el que se vive

y las consecuencias más visibles de la obesidad es una mala alimentación sedentarismo

por otra parte la obesidad está vinculada a la aparición de múltiples enfermedades como pueden ser la diabetes hipertensión arterial enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cánceres

garrantzia por eso hay que destacar la importancia de la prevención y la necesidad de detectar este problema en etapas precoces con la adquisición

el propio consejero nos decía ayer mismo que la presentación en la evaluación correspondiente a este año que estamos además en el ecuador del plan de salud que en el año dos mil veinticinco una quinta parte de la población será obesa si vemos también los datos

y participa el país vasco en este estudio

en los mejores lugares pero estamos mejor que algunas otras comunidades

de que el treinta y cuatro por ciento de los niños tienen obesidad o sobrepeso y sobre todo hay un salto importante

se ha pasado del veintiocho coma siete por ciento al veinticinco y en las niñas del veintidós coma nueve por ciento al veintiocho coma tres por ciento por lo tanto

poner fecha y poner ya deberes concretos al gobierno en relación a la elaboración de la estrategia de alimentación saludable

parte el plan de obesidad infantil yo quiero agradecer la disponibilidad primero del grupo que apoya al gobierno que obviamente también ha entendido que era oportuno poner estas fechas aunque es cierto que como señaló el consejero era intención de acometer y poner en marcha estos planes a lo largo de esta legislatura pero también sabemos y aprovechando que está el señor lehendakari aquí algunas leyes importantes o proyectos de ley que este gobierno quería impulsar la pasada legislatura se quedaron sin aprobarse

más larga en el tiempo pero nos parece oportuno que dado que prácticamente va a coincidir la

con también la vigencia del plan de salud que se puedan implantar estos planes en la medida de lo posible lo antes posible también por lo tanto hemos instado al gobierno en un acuerdo por unanimidad también agradezco la disposición del resto de los grupos que han entendido que este problema había que abordarlo con medidas concretas líneas de actuación concretas e instamos al gobierno vasco a elaborar una estrategia de alimentación saludable con diferentes líneas de actuación y medidas concretas

primero elaborar la estrategia de alimentación saludable y luego una vez que esté elaborada esta estrategia de alimentación saludable

elaborar el plan de obesidad infantil con medidas basadas en la información educación sanitaria

y sobre todo con la intención de concienciar a la sociedad y establecer pautas de actuación para su prevención también hemos incorporado otro

interesante que era abordar este asunto desde una forma integral y para ello era importante trabajar en los distintos ámbitos que yo he señalado también

y demás por lo tanto satisfacción y esperemos que esta vez el gobierno sea diligente que esperamos que sea así lehendakari y por lo tanto cumpla los plazos previstos tanto para la elaboración de esta estrategia como el plan de

egokia eman behar diogula como sabemos existen múltiples factores de riesgo para que un niño o adolescente desarrolle sobrepeso u obesidad

así las influencias conductuales suelen perdurar entre generaciones puesto que los hijos heredan

normas culturales hábitos familiares alimenticios y de práctica de actividad física también podemos hablar del entorno construido lo que la organización mundial de la salud llama entorno obesogénico es decir la disponibilidad a comprar alimentos altos en grasas saturadas azúcares o sal y o la falta de infraestructuras y oportunidades para practicar actividad física en el lugar de residencia junto además a la mayor tendencia al sedentarismo

en el plan de salud dos mil trece dos mil veinte los jóvenes entre quince y veinticuatro años

nos dan estas cifras los chicos son sedentarios

mientras que las chicas desgraciadamente en un cuarenta y cuatro coma uno por ciento el objetivo para el dos mil veinte de este gobierno vasco es limitar

por un lado impulsar acuerdos interinstitucionales y en colaboración

para la reducción de azúcares grasas saturadas y sal en alimentos preparados

en el tercer indicador del plan de salud dos mil trece dos mil veinte nos aparece el indicador contenido de sal en menús escolares

por día y el departamento de salud como objetivo dos mil veinte quiere conseguir disminuir reducir el contenido de sal en los menús a cinco gramos por día no nos dice cómo pero esperemos que todos pongamos las medidas suficientes para conseguirlo

enmienda de transacción también añadíamos regular en el ámbito de sus competencias la publicidad de los alimentos para no generar mensajes contradictorios de educación nutricional en los niños y adolescentes así como estudiar la exclusión

durante el horario infantil en televisión y radios públicas y como último punto

añadía la prohibición expresa de publicidad de refrescos

honako puntuak aipatzen ditu osasun mundu erakundeak elaborar reglas sobre la promoción de bebidas y alimentos complementarios para limitar el consumo por parte de lactantes y niños pequeños

azúcar y sal también indica isiltasuna mesedez que se debería eliminar en entornos escolares

de alto contenido calórico y bajo valor nutricional ez naiz gehiago luzatuko laburbilduta

efectivamente este es un tema en el que hay unanimidad y por tanto no voy a bajar a la tribuna a repetir los argumentos que quienes me han precedido en el uso de la palabra

el señor darpón respondía que ya estaba trabajando en esa estrategia que hoy recoge la enmienda que hemos conseguido transar

en un medio de comunicación se hablaba de un informe de unicef en el que hablaba que de la exclusión social la pobreza infantil también tenía el tema de la obesidad

es verdad que euskadi tiene unos datos en lo que tiene que ver con la obesidad infantil mejores que el resto de españa pero también es cierto que es un tema que va creciendo según van

en su primera comparecencia es uno de los puntos que recoge el acuerdo de gobierno firmado por el partido nacionalista vasco y por el partido socialista por eso lo entendemos como una prioridad que ya se marcaba al comienzo de la legislatura no tenemos ninguna duda que se va a cumplir con los puntos que hoy hemos firmado en la enmienda y bueno pues felicitarnos por el acuerdo y esperaremos

en breve espacio de tiempo nos puedan venir al parlamento a explicar los logros de la iniciativa nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

la formación profesional en nuestra sociedad tanto como en nuestro país sigue estando poco prestigiada socialmente menos conectada con el mundo empresarial de lo que debiera y todavía lejos de converger con los mejores sistemas de educación

y es en consonancia con esta visión por lo que nos hemos propuesto adaptar la normativa de formación profesional configurándola en la ley de formación profesional del país vasco para que ya

a los cambios sociales y sea integrador del sistema de educación y de empleo estamos convencidos de que avanzar en el proceso de construcción europea de una formación profesional de calidad es la mejor respuesta que podemos dar a la crisis económica y sobre todo a la creación de empleo

es una apuesta estratégica la mejora constante de nuestro sistema de fp debe ser una prioridad porque la formación profesional es un factor clave de empleabilidad

de desarrollo económico sabemos que en euskadi como en el conjunto de europa en un futuro próximo se va a requerir un mayor número de personas con cualificación media o alta al tiempo que disminuirán los empleos para personas con bajos niveles de cualificación para nosotros siempre ha sido muy importante la formación profesional y trabajar en ella

hemos trabajado y considero que con acierto en la ley de formación profesional con el departamento de educación siendo ya consejera isabel celaá y continuado por el siguiente gobierno creo que ningún año de legislatura ha quedado sin que este tema se trate en el parlamento vasco

construyendo unos detrás de otros y componiendo el puzle es una ley que nos ha requerido mucho trabajo

con la colaboración de todos los agentes educativos haciendo hincapié en las características que más nos preocupaban como pueden ser contribuir a la mejora de la formación profesional que prepare al alumnado de forma integral y le permita acceder con éxito

o conectar con el resto de niveles educativos el aumento de plazas y perfiles para que las personas que lo deseen puedan acceder a las enseñanzas de formación profesional

la integración de la formación para el empleo y la formación dentro del sistema educativo

adquiridas a través de la experiencia laboral estuvimos en la legislatura anterior comprometidos con la formación profesional

en un tema central de nuestro acuerdo de gobernabilidad para esta legislatura en el acuerdo

y nos comprometimos a hacerlo en los seis primeros meses de gobierno una ley que he de decir tiene una gran parte del contenido del programa de educación del partido socialista

una demanda que conjugue el acercamiento de la oferta al mundo productivo

la sociedad del conocimiento requiere una formación profesional que se configure como un verdadero proceso de formación

ha dejado de ser una etapa previa a la inserción laboral para convertirse en el acompañamiento necesario

y al desarrollo de la productividad por todo ello quiero felicitarnos

en cuanto a la formación profesional y cuando las cosas se hacen bien como es el caso

no quiero terminar sin antes decir que agradezco también la voluntad de euskal herria bildu con su propuesta de enmienda a la ley pero sinceramente no entiendo muy bien a qué viene porque entiendo que es una ley poco articulada demasiado genérica y sobre todo señora ubera falta de consenso con los agentes educativos

no entendemos cómo habiendo un texto articulado trabajado y desde luego no poco consensuado con los agentes educativos

con amplitud suficiente y rigor jurídico presenten otra alternativa que a nuestro entender carece de sentido por ello les agradezco su voluntad su esfuerzo y su interés

estas son las razones que llevan a la necesidad de desarrollar una ley específica en este campo que complete la legislación propia vigente en la comunidad autónoma de euskadi

a los que va a tener que enfrentarse con el objetivo de hacer realidad un modelo que permita mejorar la empleabilidad de las personas y la competitividad de las empresas en entornos de gran complejidad una ley que dote a euskadi de los instrumentos que le permitan afrontar de forma solvente los retos planteados por nuestro tejido productivo y las tendencias que en su seno apuntan hacia nuevos tipos de empleo que requieren de una mayor preparación

para ello euskadi necesita un sistema de formación profesional flexible con capacidad para adaptarse y cumplir sus fines en una sociedad y una economía en continua transformación

esta proposición de ley pretende regular el marco en el que debieran desenvolverse las políticas de formación profesional en la comunidad autónoma de euskadi por su especial significación

a los efectos de tratar que euskadi sea capaz de ubicarse en condiciones idóneas en el nuevo modelo económico que europa tiene como objetivo beraz

la presente proposición de ley introduce de forma novedosa un modelo combinado de formación profesional en el que se integran no solamente el ámbito de la formación profesional integrada

sino igualmente los aprendizajes en innovación aplicada y emprendimiento activo bi eremu horiek kualitatiboki

izango dituen ondorioak el desarrollo de la formación profesional dual en régimen de alternancia constituye un objetivo estratégico fundamental por otra parte la presente proposición de ley pretende establecer los elementos que hagan posible el desarrollo e implantación de un sistema fuerte y amplio

como a las especializaciones necesarias demandadas por el tejido productivo en general

ese proceso de internacionalización se asienta sobre tres tipos diferenciados de intervención por una parte los programas de intercambio de profesorado y de estudiantes

la oferta de actividades formativas del sistema vasco de formación profesional en otros países de especial importancia en el caso de empresas vascas con centros de trabajo en el exterior y en tercer lugar lo que se podría denominar la exportación de experiencias del sistema vasco de formación profesional a otros países

aportando el conocimiento y la experiencia existente en euskadi euskadiko autonomia erkidegoko lanbide heziketan hizkuntzen auziak erronka bikoitz bat dakar

empezamos hoy a hacer algo que yo la verdad como recién llegada a

echaba de menos para qué estamos aquí pues desde luego estamos para controlar al gobierno para proponer para censurar

estamos para una cosa que es para hacer leyes legebiltzarra gara para hacer leyes somos el legislativo y por primera vez

en este periodo de sesiones tenemos una ley que discutir o sea que hoy a nuestro grupo le parece un día

en este periodo de sesiones nos vamos a ocupar de lo que es más relevante en nuestra función que es legislar entonces nos hemos encontrado no solamente con un proyecto de ley sino con dos y me van a permitir

que diga por qué sí vamos a votar a uno y por qué no vamos a votar la admisión a trámite del segundo

al presentado por euskal herria bildu el problema que vemos nosotros con el proyecto de euskal herria bildu

toda ley cuando empieza a explicarse a sí misma declara su sitio jurídico dónde se incardina y a partir de qué consigue su legitimidad esto no sucede así en el proyecto de eh bildu y por qué

aunque muchas de las cosas que dicen pueden tener razón y esperamos que puedan ser incorporadas en la tramitación de la ley lo que ponen de manifiesto por una parte es algo que todos sabemos que el sistema tiene problemas y que hay que arreglarlos

que la propuesta que suele hacer eh bildu es rompamos el sistema y construyamos de nuevo claro romper un sistema es un movimiento muy arriesgado muy arriesgado

han producido muchísimo sufrimiento muchísimo entonces nuestro grupo prefiere

corregir mejorar aquello que se nos presenta más que romperlo y empezar de nuevo a ver qué pasa

y la inseguridad jurídica para nosotros viene de ahí no se nos explican dónde están las raíces jurídicas del proyecto

en las leyes que rigen a nivel nacional y yo entiendo que eso puede dar un poco de urticaria pero sí quiero decir una cosa el conocimiento y la acción

y mucho más costosa tanto en conocimiento como en acción

empezar ya a trescientos cuatrocientos quinientos metros de altitud que lógicamente llegaremos más lejos entonces

pero no me parece justificado luego en su proyecto el grupo eh bildu en nuestra opinión

siguiendo un tic que tienen prácticamente en todo menos en lo que se refiere a educación

que es la parte que va centros concertados es que no se puede

una cosa subsidiaria una cosa que está ahí no el cuarenta y tres por ciento

que van a formación profesional van a un centro concertado no se les puede tener manía y es más

en ese tic en mi opinión de acorralar de arrinconar

lo he visto en su intervención hau euskaldun legea eta

ubera la realidad es que un porcentaje muy alto de la población incluso teniendo unos conocimientos básicos de euskera prefiere hablar en castellano entonces si usted hace solo las cosas para los euskaldunes no está atendiendo a toda la población

eta si hay un texto legal en euskera es que no lo entiendo especialmente porque mi euskera es de la calle entonces todas esas palabras nuevas de muchas silabas de no sé qué pues no las entiendo

un esto para euskaldun etcétera etcétera consideramos que su texto está lleno de ideología

la ideología tiene que estar presente no somos iguales somos diferentes cada uno tenemos nuestros principios ideológicos pero yo no creo que una ley es el sitio

ideológicamente unas posturas su texto es muy justificativo es más bien

y un texto legal no debe ser eso

no nos gusta cómo abordan ustedes la fp básica la fp básica es por primera vez cuando metemos en el sistema de fp todos aquellos que antes terminaban la eso sin haber adquirido el nivel suficiente se ocupaban de ellos los ayuntamientos pero no estaban metidos en el sistema en estos momentos los metemos en el sistema con lo cual afortunadamente

pero es un fenómeno que tiene que ser tratado mucho mejor de como ustedes dicen

que los centros tengan que ocuparse también de la fp básica

a unos trescientos profesores que hasta ahora se han ocupado en otras instituciones de esas personas y además que han sido

profesores y profesoras que merecen un reconocimiento por qué porque se han ocupado probablemente de los estudiantes más difíciles más complicados

con un par de capotazos los meten en la formación profesional integrada y destruyen todo lo que ya tenemos mientras que en el proyecto de ley que nos presenta el grupo nacionalista y el grupo socialista tenemos plazos etcétera etcétera

luego es muy importante algo que nosotros siempre nos ha parecido fundamental y que estamos muy contentos de que se haya recogido aquí que es la presencia y la fuerza del inglés miren puede haber

pero puede haber por ejemplo médicos que en toda su vida trabajen

si para alguien es importante saber inglés precisamente es

que hacen formación profesional en un medio

que la exportación sea uno de los objetivos principales porque esto son las personas que van a ir me acuerdo que el otro día me expresé así van a ir a polonia a montar la o a polonia

y que van a tener que volver cuando la maquina no funcione y explicar por qué no funciona y hacer las reparaciones y dar un cursillo a los operarios de allí de cómo funciona si alguien necesita verdaderamente una preparación en inglés

la persona que sale de fp y ahora voy a explicar por qué por qué sí vamos a votar a la admisión a trámite del proyecto de ley

del grupo nacionalista y del grupo socialista primero dan una gran importancia a la fp dual

aquí hubo otros intentos antes pero en el formato actual es producto de la lomce

por varias razones pero una de ellas fundamental es que prácticamente alrededor del noventa por ciento

de las personas que están en formación profesional consiguen emplearse y normalmente en esa empresa en la que han estado compaginando sus estudios

primero por la empleabilidad pero es importante por otra razón que es la demografía que se quedan en euskadi que no se van que trabajan aquí que esperemos que puedan hacer su proyecto de familia aquí y que esperemos

nos proporcionen otra generación que les paguen a ustedes las pensiones a mí ya me las van a pagar pero todos ustedes que son jóvenes como no tengamos aquí

los que tienen ustedes aquí alrededor de cuarenta años lo van a tener muy difícil

la formación profesional dual es importante por la empleabilidad y por la demografía

muchísima y eso a nosotros nos satisface por lo que he dicho antes establece evaluaciones es que no hay

proceso que si no tiene una evaluación periódica pueda mejorar es una especie de autocomplacencia diseñar

que no se evalúa tiene evaluaciones y nosotros lo agradecemos es capaz de incardinarse en el marco competencial que tenemos

que empieza la carrera a quinientos metros de altitud no

sobre los hombros de otras legislaciones y tiene la posibilidad partiendo de esa altura de mejorar esa

por distintos por todo por el carácter general porque además no parte de cero reforma mejora es por lo que nosotros vamos a votar a favor de la admisión a trámite del proyecto de ley que nos presentan los grupos

haremos enmiendas creemos que también se pueden mejorar haremos enmiendas negociaremos y procuraremos aportar

nuestra perspectiva muchísimas gracias eskerrik asko de bengoechea andrea

egun on eskerrik asko desde nuestro grupo parlamentario comentar que nos hubiera gustado que se hubiera facilitado la tramitación de las dos propuestas de ley porque teníamos propuestas también para ambas

por respeto al trabajo y a la propuesta que el grupo de eh bildu había traído

más cercanos no voy a repetir lo fundamental que también para nuestro grupo es el desarrollo
de esta ley del conjunto de la formación profesional isiltasuna mesedez eskerrik asko para el conjunto

de la economía para el futuro de la inserción laboral para el futuro de la empleabilidad de la juventud vasca pero sí que nos gustaría señalar en estos

en la propuesta de ley que se empieza a tramitar y algunas de las propuestas que también desde nuestro grupo parlamentario vamos a realizar

coordinado con otros departamentos diputaciones y agencias de desarrollo

y no solo en su caso sino que nos parece fundamental que sea siempre con la participación de los agentes sociales pensamos y defendemos una formación profesional que tiene

pública como una garantía de igualdad de oportunidades para el conjunto de la ciudadanía por tanto nos parece fundamental ampliar la cobertura de la red pública y no seguir perdiendo

sentido nos parece fundamental una formación profesional al servicio de los intereses del conjunto de la sociedad

a lo que llevan como el tema de la colaboración público privada que no estamos en contra de colaborar con las empresas sí que se tiene que hacer con

garantías porque desde el gobierno tenemos que liderar el cambio de ese modelo productivo tenemos que liderar el cambio de este modelo de formación profesional el cambio hacia una economía todavía más basada

exigencia por parte del los poderes públicos hacia las mismas y mayor control de lo que hacen una fp

a nuestros pueblos a nuestros barrios y a nuestro desarrollo de las comarcas al desarrollo local pensamos que se puede mejorar en ese sentido en la tramitación parlamentaria propuesta que desde el gobierno nos trae lo echamos en falta y yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo para poder trabajar y poder llegar a consensos en ese sentido decía también con participación fundamental de los órganos colegiados de los agentes sociales es curioso

entre comas en cuanto a la participación de los sindicatos cuando pone y en su caso nos parece fundamental que sea

de esta nueva ley la participación de los sindicatos en el desarrollo de la formación profesional en cuanto

hay grandes titulares acerca de esta nueva modalidad de pero lo que tenemos y lo que queremos dejar claro en las enmiendas que haremos es que la formación profesional dual jamás podrá sustituir a un trabajador de las empresas porque es lo que en muchos casos nos tememos que está pasando y hay denuncias también sindicales en torno a eso tiene que ser contratos exclusivos de formación con derechos y que

de trabajo porqué no de esa modalidad porque esa modalidad que puede ser

de la sociedad no puede encubrir prácticas de explotación laboral y prácticas donde se estén vulnerando los derechos laborales

en ambas propuestas creo que aunque ahora solo se va a tramitar una de ellas pero creo que podemos trabajar a través de las enmiendas se habla yo creo que

manera escasa pero se puede mejorar en el tema del profesorado pensamos que es

profesional pensamos que hay que dotarles de mayor formación dentro del horario laboral y de un mayor reconocimiento por ir acabando porque se me acaba el tiempo pensamos también que hay que incluir cláusulas de transparencia

de las materias porque sabemos que dentro de las

se están produciendo situaciones de vulneración de derechos

laborales por tanto mostramos de nuevo

voto afirmativo a la tramitación de la propuesta de ley nos hubiera gustado que hubieran sido las dos y trabajaremos para intentar llegar a una ley de formación profesional adecuada para la sociedad vasca y adecuada también para la empleabilidad y para

azpimarratu dute adibide bat esateagatik esan que es una red ciudadana que trabaja en el interior de las cárceles y de la que

entre ellas se encuentran entidades que realizan un trabajo muy importante en las prisiones como por ejemplo la cruz roja han hecho una rueda de prensa esta semana y en esta rueda de prensa han remarcado la necesidad de

porque entienden que cuando se lleve a cabo esta transferencia habrá que sumar a la materia las políticas sociales de empleo servicios que ya son competencias del gobierno vasco y que pueden

integral y unificada a las personas en situación de prisión

para que las instituciones los partidos políticos los agentes sociale hagan dejación de sus funciones

por todas estas razones y también porque creemos que desde el punto de vista de la construcción de un estado al que euskal herria bildu quiere llegar también es importante las transferencias de prisiones

hay que hacerlo en este parlamento y hay que hacerlo cuanto antes

estemos preparadas para dar una respuesta a la situación gure taldeak azterketa egitea

de fuera de las instituciones que han participado y han hecho un debate parlamentario con las entidades sociales sobre cuestiones

cómo se puede hacer es decir la sociedad ha ayudado al parlamento y ha ayudado al gobierno a poner otras medidas encima de la mesa

queremos analizar la situación actual queremos ver qué tipo de política penitenciaria queremos desarrollar qué instrumentos necesitamos para hacerlo queremos diseñar y tener una política penitenciaria propia

y para las necesidades de las personas que forman parte de nuestra comunidad a euskal herria bildu no le gusta

de política penitenciaria con las cuestiones cómo se llevan adelante y no queremos trasladar ese modelo como está

en el país vasco creemos que debemos de dotarnos

no puede ser únicamente un traspaso de infraestructuras y luego no tener opción de hacer nada diferente para mejorar las condiciones de las personas

cuál es entonces el problema que puede haber para discutir de todo esto en el parlamento porque si lo que pensamos es que una ponencia no sirve para hacer este tipo de análisis y para hacer esta discusión pues entonces igual tenemos que plantearnos quitar las ponencias del reglamento pero nosotras pensamos donde se tiene que hacer este debate el lugar donde se tienen que hacer las cosas porque el legislativo también tiene cosas que decir dentro de las capacidades que tiene es

somos conscientes de que las personas que cumplen condena en su mayoría procedentes de ámbitos de exclusión social y presentan necesidades específicas que requieren modelos especializados medios especializados atención especializada

en todas las materias que les afectan y esa también es nuestra responsabilidad y sobre eso también tenemos que hablar y tenemos que ver qué queremos hacer

ere emakumeak eta kartzela tenemos unos centros penitenciarios en el país vasco

donde la atención y la asistencia que se les hace no es desde nuestro punto de vista adecuada y no responde a sus necesidades tendremos que ver

tendremos que pensar y diseñar y ver qué política vamos a llevar en relación con las madres con hijos con las madres lactantes es decir tenemos muchos muchos temas encima de la mesa y muchas

no entenderíamos y no entendemos que no haya un posicionamiento favorable de todos los grupos de esta cámara a hacer un debate de estas condiciones y no lo entendemos nosotros no lo entenderíamos y creo que tampoco lo van a entender los agente sociales de hecho

hoy en este pleno estuvieron el viernes pasado en unas jornada que realizó y este tema salió y salió esta cuestión y se puso encima de la mesa la cuestión de la ponencia y los miembros de esta red planteaban la necesidad de que esta ponencia se hiciera y nos decían que les parecía interesante y que estaban dispuestos a participar

tampoco entenderían todos estos grupos que este parlamento cuando quieren participar cuando quieren aportar cuando quieren hacer una política penitenciaria diferente para todos y todas las personas en situación de prisión

a poder entrar a hacer este análisis y el planteamiento más adecuado para nosotras es este

en este parlamento pero evidentemente cuando uno

la creación de una ponencia en este parlamento vasco tiene que ver en primer lugar cuál es el objeto de dicha ponencia y en segundo lugar si existe necesidad de que se constituya dicha ponencia en un primer momento y además se ha puesto así en ese orden

que tenía por objeto el análisis de la situación actual y de las propuestas en relación con la transferencia de las instituciones penitenciarias la verdad es que si nos atenemos a este punto específico

porque la transferencia en la competencia de prisiones será algo a decidir es verdad que está en el acuerdo de gobierno entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

será mediante un acuerdo entre ellos cuando se decida esta transferencia por lo tanto existe la fórmula dicen que la han utilizado que luego contesten de manera

de volverla a presentar en caso de que las explicaciones no sean las adecuadas pero como digo

en el congreso de los diputados como al gobierno vasco aquí cuándo

el tiempo y la fórmula para hacer la transferencia y si lo que se pretende como se ha dicho aquí es para hablar de una nueva legislación penitenciaria y de una nueva política penitenciaria

se han también reiterado aquí son indisponibles para el gobierno vasco cuando en su caso tengamos la transferencia

claramente entre la competencia ejecutiva en materia penitenciaria y la legislación penitenciaria

es competencia exclusiva del estado tanto la legislación penitenciaria como la legislación penal es cierto que con arreglo a nuestro estatuto de autonomía en su artículo diez punto catorce euskadi puede ejercer la competencia en la

régimen y funcionamiento de las instituciones de protección y tutela de menores penitenciarios y de reinserción social conforme a la legislación civil penal y penitenciaria que como digo es competencia del estado con arreglo del

penitenciaria del estado por tanto aspectos que se mencionan en la iniciativa como lo relativo a modificaciones en el ordenamiento jurídico como lo relativo

no son competencia ni lo van a ser a pesar del traspaso de euskadi no entran en aquellas cuestiones que se puedan transferir como tampoco entran que

respuestas distintas al delito ello constituye legislación penal

que repito es competencia exclusiva del estado entonces nosotros podemos crear una ponencia y podemos traer aquí distintos expertos que nos digan cuáles serían

otras posibles respuestas más óptimas para actos delictivos pero no tendríamos competencia para en su caso modificar esas respuestas distintas al delito porque como digo eso

o las fórmulas de tratamiento pero en ningún caso reitero la legislación penitenciaria en cataluña es verdad que en su estatuto contemplaba esa transferencia se realizó en el ochenta y tres y luego fue

en el estatuto de cataluña actual el que trae origen

en su artículo ciento ochenta y seis adopta un tratamiento más amplio del tema aunque no altera lo fundamental que yo les estoy exponiendo yo aquí

y aspectos referidos a la planificación gestión administración y organización aunque también he de decirle que tener la competencia no siempre

o a la ejecución de esta competencia en cataluña con relación a euskadi en el año dos mil once la secretaría general de instituciones penitenciarias firmó un convenio de colaboración institucional con el departamento de justicia e interior del gobierno vasco mediante el cual a modo de encomienda de gestión

se pasaban a dicho departamento para realizar las gestiones de tramitación seguimiento y ejecución de las mismas que fueran dictados por los juzgados de lo penal del país vasco

en concreto y de conformidad con lo dispuestos en el artículo veintiuno del decreto ciento ochenta y ocho barra dos mil trece

la dirección de justicia es competente para ejecutar en el ámbito de su competencia la legislación penal y penitenciaria en coordinación con el resto de actuaciones del gobierno en dichos ámbitos la dirección de justicia en el ejercicio de estas competencias y dentro de las limitaciones existentes sigue las recomendaciones realizadas por el parlamento europeo

reorganización y penas de sustitución que insta a los estados miembros a aplicar el conjunto de las disposiciones de la normativa penitenciaria del consejo de europa es decir

gestión de servicios sanitarios y educativos y también con arreglo a nuestra regulación actual el gobierno vasco diputaciones y ayuntamientos como también lo reconocen las propias entidades a las que usted ha hecho referencia pueden atender las necesidades de atención

por lo tanto hay que exigir la responsabilidad a esas

que tenemos ya en materias sanitarias de educación de empleo de políticas sociales etcétera porque esas asociaciones a las que usted ha hecho referencia dicen esto o

hay mucho que decir con las competencias actuales que antes de esa transferencia también tenemos mucho que hacer y mucho que decir y por otra parte está el servicio vasco de gestión de penas que

que se encarga por velar en nuestra comunidad del efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad de las suspensiones de la ejecución de las penas privativas de libertad

de todos los juzgados y tribunales de euskadi por qué le hago referencia a todo esto porque parece que cuando venga se produzca la transferencia

no hay nada esto es un solar en el que nada se ha hecho y se tiene que empezar de cero y eso no es así eso no es así es verdad que en su comparecencia

en la que la reeducación y la reinserción social se constituyeran como un horizonte esencial y que fuera una verdadera política de rehabilitación

no puede estar más de acuerdo con ello pero es que eso viene establecido en nuestra propia constitución el objetivo de la pena es precisamente

ese sistema de grados del sistema penitenciario español se adecúa a lo establecido al tratamiento penitenciario de reglas mínimas de las naciones unidas

y la recomendación ochenta y siete barra tres del consejo de europa sobre normas penitenciarias europeas y ambas recomendaciones

incluso interpretadas de forma más progresiva que

en nuestra legislación penitenciaria por lo tanto estimamos que tenemos los datos suficientes para que cuando en su momento por un acuerdo entre los dos gobiernos se produzca ese traspaso de las instituciones penitenciarias se puedan aquí ejecutar el cumplimiento de las penas y cumplir ese mandato constitucional establecido en el artículo

ni para ver cuándo se produce y cómo se produce la transferencia ni tampoco para ver qué es lo que hay que hacer porque hay información cosa bien distinta es lo que usted ha dicho que

a posibles experiencias o a posibles aportaciones de asociaciones no porque

todos los grupos las hemos podido oír y las puertas de cualquier comisión están abiertas para todo aquel que quiera venir a hacer una aportación pero eso no quiere decir que haya que crear una ponencia específica ni para ver cuándo se produce la transferencia o cómo se produce la transferencia ni en su caso

a este gobierno porque no son competencia del gobierno vasco sino que son competencia exclusiva del estado por todo ello nuestro grupo va a votar en contra

y es que nosotros sí sabemos qué hay que hacer con las competencias penitenciarias sí sabemos

cómo se les garantiza todos aquellos derechos de los que no han sido privados por las sentencias que les condenan los socialistas sí sabemos cómo queremos afrontar las políticas de reinserción que es lo que ya está previsto en nuestra constitución y los socialistas sí sabemos cómo hay que ofrecer fórmulas que sin sustituir a la justicia penal

sabemos que es posible colaborar con el gobierno de españa que es el que

en ámbitos penitenciarios para conseguir lo que la constitución establece en su artículo veinticinco y que no es otra cosa que la reeducación y la reinserción social es más

que fue la secretaria general de mi partido idoia mendia quien le propuso al lehendakari contar con un departamento específico para esta y otra materia la de trabajo

que esas competencias cuando se logre el acuerdo con el gobierno de españa

bien y le digo que sabemos hacerlo en lo que nos compete nosotros no concebimos otra política penitenciaria que no sea una política social y de rehabilitación y en lo que no nos competa vamos a ser agentes activos para buscar complicidades y acuerdos con el gobierno de españa para lograr una política penitenciaria eficaz para ese fin que tiene que ser la reeducación y la resocialización

el viernes con la red de entidades que trabajan el ámbito penitenciario de euskadi y nafarroa

el foco de sus preocupaciones porque yo le puedo asegurar que ese es el centro de la preocupación y del modelo que quiere establecer el departamento de justicia cuando se acuerde

ese y no otro y agradezco a la proponente esta cuestión porque hasta ahora en el debate público el foco de esta materia se ha puesto siempre o muchas veces

que no estoy cuestionando una preocupación general digo que se ha puesto el foco de la opinión pública en esta parte y a veces eso ha lastrado o ha visto lastrado las necesidades que tienen la población reclusa en general así que aprovecho para dejar claro que la idea en la que pensamos no es en atender las necesidades de una parte sino de todas esas personas que han agredido

grado de gravedad a otros ciudadanos y que por tanto el objetivo de la política penitenciaria tanto desde la legislación como desde la gestión de los centros de reclusión es compartido y es que sea cual sea la razón que conduce a alguien a la cárcel cuando cumpla su condena y vuelva a pisar la calle lo haga reconociendo su error y con la firme voluntad de no volver a delinquir eso para nosotros es fundamental

para hacer una política de intervención integral en los centros penitenciarios porque la administración autonómica aun a pesar de no tener la competencia trasferida y se les ha recordado ya aquí interviene el ámbito sanitario

y en el social hace dos legislaturas lo ha dicho también la portavoz del partido popular con idoia mendia en el departamento de justicia es verdad que el gobierno no consiguió el acuerdo de la transferencia no voy a recordar en este momento porque no es cuestión de escusas las reticencias que existían cuando todavía

pero eso era un dato objetivo a pesar de no conseguir la trasferencia no renunciamos los socialistas a esta materia porque

la señora llanos en su intervención verdad y que nos hacíamos de facto responsables de la atención a la población reclusa y nos hacíamos responsables también de su reinserción

y otro que era para gestionar las penas que se cumplen fuera del ámbito penitenciario con trabajos en beneficio de la comunidad entonces alguien nos podría preguntarse y a esta respuesta también dio contestación el viernes en la mesa redonda para qué nos vale la trasferencia si ya prestamos los servicios

a nuestra comunidad pero sobre todo porque queremos hacer una apuesta integral

absoluta de la población reclusa para ello

que va a corresponder al departamento de justicia y en el que tiene que colaborar en el ámbito que le competa la secretaria de convivencia y derechos humanos porque efectivamente tendrá incidencia o así nosotros lo pretendemos en la reinserción también de quienes han formado parte de bandas terroristas

en todo aquello que es nuestra competencia y colaboración plena para buscar acuerdos y acompañar a quienes siguen teniendo la competencia sobre decisiones penitenciarias que en este caso va a ser el gobierno de españa creo creemos lo socialistas que otra política penitenciaria es posible somos y nos manifestamos partidarios del acercamiento de presos

seguimos pensando que merece la pena explorar la vía de cumplir la ley para buscar que quienes han delinquido y atentado contra la sociedad se quieran reencontrar con estas sociedad asumiendo que cometieron un error asumiendo el daño causado y seguimos pensando que para el conjunto

hay todavía un camino que recorrer aunque hay experiencias del pasado que han demostrado

las penas tienen que estar orientadas a esa reeducación y reinserción

no creemos que nos haga falta esa ponencia lo que nos hace falta es que todos estemos en la misma dirección hacia el mismo

no creemos en el formato de la ponencia creemos en el debate que se tiene que realizar pero en este momento ya existe un grupo de trabajo para el análisis y definición de las líneas estratégicas de un modelo penitenciario en euskadi con la conformación también de unas jornadas abiertas en las que habrá posibilidad

una vez realizado este análisis lógicamente por parte del gobierno tendremos oportunidad los grupos parlamentarios de conocerlo de debatir sobre el mismo y de realizar aportaciones para conseguir ese fin que todos décimos tener que es resocialización y reeducación de la población reclusa en general una matización sí que le que le quería realizar en la mesa que estuvimos de esen

de entidades que trabajan en el ámbito penitenciario solamente una persona de la fundación signum fue la que hizo la mención y nos preguntó por la ponencia y ella lo hacía porque creía en un trabajo conjunto del tercer sector con el órgano ejecutivo en la visibilidad del trabajo que realizan y de su existencia

y en la interrelación entre quienes pueden gestionar y quienes están en contacto directo y ahí lo que les trasladamos nosotros es que para nosotros importante era el debate pero no el formato

en el que solamente participan en una primera intervención que nos parecía muchísimo más oportuno una mesa de trabajo con una interrelación permanente con el ejecutivo y desde diferentes ámbitos y por ello en esa mesa de trabajo en ese grupo de trabajo las organizaciones del tercer sector están incorporadas

nos ha comentado y para los que también y ellos nos dijeron porque trabajan con ellos ya tienen también algún tipo de programa

que lógicamente se tendrán que mejorar para que tengamos una posibilidad integral de que las penas o el cumplimiento de las penas sean con el objetivo que establece la constitución que no es otro que la reinserción y reeducación de los

andrea lehendakari sailburuok compañeros parlamentarios compañeras parlamentarias

pues bueno parece que la transferencia de la gestión de prisiones llegará a euskadi más pronto que tarde la consejera socialista

es compartir el debate y lograr el máximo consenso político y social para abordar con éxito esta compleja gestión por eso nos pareció sugerente

y la vamos a apoyar pero el pnv no está de acuerdo no sabíamos que el psoe y el pp no estaban de acuerdo le voy a dedicar más tiempo al pnv

en una ponencia específica en el marco de la comisión de trabajo y justicia

la enmienda y me comunica iturrate ha dicho que no el pnv no firma la verdad es que me quede sorprendido porque el señor iturrate

y un buen parlamentario es vecino del casco viejo bilbaíno que le da un valor añadido

hombre pues no creo sobre todo pensando que la responsabilidad de su gestión corresponde a la consejera socialista

qué pasa que los temas son sencillos de abordar o no hace falta consenso social y político para tocar estos asuntos en nuestro país

la posibilidad de intervenir en la gestión entre otras cosas de las clasificaciones destinos y régimen interno de las prisiones e integrar los procesos de gestión con los ya transferidos

socio laboral no parecen sencillos el pnv no quiere negociar debatir contrastar un modelo penitenciario propio en euskadi

un sistema de ejecución penal que no aumente la marginación ni cronifique los factores que llevan a delinquir a la mayor parte que pueblan nuestras prisiones y que vuelven a ingresar no me lo creo necesitamos pues ponernos de acuerdo sobre cómo organizar nuestros modelos de reinserción social para presos y para presas tiene el pnv claro qué hacer con la proyectada cárcel

nosotros por ejemplo creemos que con una cárcel para la cumplimentación de penas es suficiente en euskadi

setecientos ocho celdas modernas consideramos que con organizar

nuevos centros de inserción social para atender a las personas privadas de libertad que vayan progresando

es suficiente para los internos e internas con residencia en araba sería suficiente en pisos de acogida ubicados en gasteiz

puede haber verdaderas sublevaciones parecería que cierto consenso social con las entidades de iniciativa social y con los partidos políticos en los ayuntamientos en los municipios

hay una propuesta de decreto para normalizar los procesos de mediación en las resolución de conflicto y en reconocimiento de víctimas

no parece sencilla parece conveniente que este debate vaya acompañado de un proceso profundo de conciencia social de concienciación social para que no solo importe qué se transfiere sino también cómo se transfiere

para qué se transfiere entendemos que la asunción competencial debe representar una oportunidad para hacer que la sociedad vasca se responsabilice del uso que se hace en su nombre de la intervención penal

quiere hacerlo el pnv solo es un marrón yo les deseo suerte

las entidades de iniciativa social con las que tuvimos el gusto de estar

joseba carmelo barrio el viernes en un debate interesantísimo más de veinte entidades

porque sobre él descansan las posibilidades de que la persona en prisión reciba un apoyo efectivo

el conocimiento de su labor por parte de los poderes públicos vascos así como consolidar la realidad penitenciaria como parte

es fundamental integrar la atención y el acceso

fundamental especialmente en la defensa de los derechos individuales de los presos y presas y especialmente de los grupos más vulnerables mujeres la mayoría menores de treinta años la mayoría analfabetas la mayoría con hijos

inmigrantes la mayoría drogodependientes

personas de etnia gitana problemas culturales problemas de comunicación problemas

en las formas de intervención social y por otro lado las presas y los presos vascos

otro modelo de gestión de asignación de grados y permanencia es necesario un cambio en el tratamiento penal de los derechos del terrorismo

ni siquiera se me ha ocurrido a mí su acercamiento a las cárceles vascas para favorecer su reinserción social

de los penados favoreciendo sus vínculos sociales veinticuatro años de cárcel veintiséis años de cárcel veintisiete años de cárcel

salen destrozados y destrozadas por mucho

veinte años diecinueve dieciséis veinticinco a dónde van con qué capacidades de reinserción social con qué propuestas de reinserción social va su integración y el régimen normal de internamiento

desde la consejería de trabajo y justicia abordar estos asuntos con consenso político con consenso social eliminar las disposiciones especiales relativas a grupos y delitos terroristas que impiden la concesión del régimen del tercer grado

integrar efectivamente la atención a la salud de forma programada e integral insisto en el concepto de los consultorios de la cárcel

sin esperas innecesarias con las medidas de seguridad suficientes ni más ni menos

con programas con los y las internas y con continuidad en la atención a la salida en cualquiera de sus formas

me quedan unos cuantos temas a cual más complicado y difícil de abordar y siempre necesitados de procesos de consenso político y consenso social

estos y otros temas el pnv no está de acuerdo yo estoy convencido que el pnv tiene posiciones pensadas y debatidas sobre todos estos temas pero por qué no nos lo cuenta a los demás digo para aprender

áreas de gestión política y de influenciar poder contrastar nuestras opiniones

conocemos su pragmatismo para llegar a acuerdos bilaterales con el pp con el psoe con bildu si fuese el caso o con nosotros porque esto es muy largo todavía

ekimen berria da zer aldatu da ordutik hona qué cambios se han producido desde entonces desde febrero de dos mil catorce podríamos mencionar el desarme de eta el ocho de abril tras más de cinco de años desde su alto al fuego

del retorno del terrorismo de eta y a la espera de su disolución ya no hay excusa injustificable por cierto desde nuestro punto de vista para completar la transferencia ni para recomponer el estado de normalidad penal y penitenciario otra novedad relevante quizás la principal novedad

a la reclamación histórica nacionalista del traspaso de la competencia lo cual todo sea dicho de paso nos parece muy positivo e importante y lo que sigue igual

reconocimiento del daño causado y que fue injusto y que la transferencia no ha sido completada y que las posiciones de las dos partes de la relación bilateral siguen en los mismos términos el pnv este parlamento y el gobierno vasco siguen reclamando la transferencia

artículos diez apartado catorce y artículo doce apartado uno casi treinta y ocho años después de su aprobación

el acuerdo de gobierno entre el pnv y el partido socialista para la presente legislatura dos mil dieciséis dos mil veinte

tras la enumeración de las transferencias pendientes hasta treinta y cuatro establece el compromiso de los firmantes de trabajar para que en la agenda de relaciones bilaterales a entablar con el gobierno central

y negociación de las transferencias relativas a los centros penitenciarios y la posición del gobierno español sigue siendo la misma la de negar este traspaso

es posible lo cual antes no lo era nos decía el pp

entendemos que es exigible y así lo hacemos el cumplimiento del estatuto fuera de toda coyuntura política no se puede incumplir consciente y deliberadamente

y luego exigir a otros que lo cumplan a rajatabla ondorioz

hecha esta introducción que creíamos necesaria nuestro grupo va a votar en contra

en primer lugar el decreto ochenta y cuatro barra dos mil diecisiete de once de abril por el que se establece la estructura orgánica y funcional del departamento de trabajo y justicia

planificar el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de instituciones y establecimientos penitenciarios por lo tanto es el gobierno el competente para dicha planificación y lo gestionará como entienda que es más oportuno es su responsabilidad

un grupo de trabajo aquí no se trata como le he oído decir de ponerse medallas

le corresponde hacer lo que normalmente tiene que hacer no le corresponden medallas normalmente se ponen medallas cuando alguien hace algo que no le corresponde hacer las transferencias pendientes son cuestiones

el que esté en cada momento y el gobierno vasco de forma bilateral en la comisión mixta de transferencias por ello no creemos que la creación de la ponencia propuesta pueda contribuir acercar la transferencia el parlamento no debe suplantar al gobierno

que el informe que elaboraría esa ponencia sería de propuestas para decirle al gobierno cómo tiene que hacerlo y el parlamento tiene otras vías o mecanismos en su función de impulso y control del gobierno

y es lo que está haciendo y debe hacer compartimos con usted

no tenga ninguna duda sin tener la transferencia el gobierno vasco lleva años trabajando para mejorar desde todo punto de vista las condiciones de las personas con el objetivo claro del artículo veinticinco punto dos de la constitución de reeducación y reinserción social hablaba de otras fórmulas diferentes que quieren implantar en euskadi

ya se han puesto en marcha fórmulas diferentes la justicia restaurativa en los programas de justicia juvenil que como decía el señor uria el otro día nos hacen estar a la cabeza en el estado en cuanto a reinserción de menores infractores

social y penal los trabajos en beneficio de la comunidad que hablaba la señora castelo con acuerdos entre el gobierno vasco y eudel también loa talleres restaurativos y encuentros entre víctimas y autores los itinerarios socio laborales para personas presas

imaginación e ideas se tienen decía también que las instituciones deben trabajar en favor de los derechos de las personas también de los presos al pnv

ha defendido siempre la máxima de todos los derechos humanos para todas las personas como le digo lo defiende ahora y lo defiende hace cuarenta años también y durante ese tiempo

hablaba también de la jornada del pasado viernes con las entidades sociales en ámbito penitenciario organizado por la plataforma esen y aquí sí quería manifestar se lo ha dicho la señora castelo yo voy a ser más claro que no se tergiverse lo que allí se habló

de las más de veinte que se realizaron a los que participamos en la cual y está grabado con lo cual se puede comprobar

dijo qué valoración hace el resto de grupos parlamentarios de la propuesta de eh bildu de crear una ponencia esa fue la pregunta yo creo que una pregunta interesante y de modo objetivo las conclusiones que se nos entregaron al final

en ningún caso hacen mención a la necesidad de la creación de la ponencia a la que usted ha aludido sí que es cierto que esas asociaciones esos agentes sociales que trabajan día a día con las personas que están prisión y hacen una labor impagable

y como les dijimos reconocemos que son interlocutores válidos necesarios e imprescindibles finalmente creemos que no es necesaria una ponencia para cada una de las transferencias pendiente de transferir hablábamos antes de treinta y cuatro que se decía en el acuerdo de gobierno

ha sido por acuerdo de todos los grupos y como ve no es el caso hablaba de cataluña que han tomado como modelo

debatía esta materia pues como bien sabe esta legislatura se han constituido y o retomado dos nuevas ponencias en este parlamento

hablaba usted que la aspiración de bildu es a un estado estado vasco y que dentro de ese estado vasco son importante las políticas penitenciarias pues ahí tiene un foro donde debatir

está la ponencia de memoria y convivencia donde uno de los aspectos a trabajar junto con las víctimas la memoria y la convivencia y derechos humanos será la política penitenciaria

decía eh bildu que es necesario abrir un debate sobre la realidad penitenciaria uno dos tres cuántos debates sobre realidad penitenciaria hay que abrir en este parlamento por lo tanto

ámbitos en este parlamento donde cada grupo y los agentes implicados pueden tener voz y plantear sus propuestas en esta materia señor uria yo no soy del casco viejo soy de la villa más antigua de bizkaia pero le puedo decir que el partido nacionalista vasco

ni sobre cualquier otra cuestión le parecen pocos debates los foros en los que están abiertos para hablar de realidad penitenciaria y principalmente porque no depende de nadie a la hora de tomar decisiones

cuando hacemos un debate en el cual el gobierno del estado español tiene que perder algo de su soberanía algo de su poder

pues el partido popular siempre pone muchos problemas encima de la mesa y no me parecía extraño antes de escuchar su intervención

con el planteamiento de la ponencia pero sí le quiero decir dos cosas

que somos conscientes muy conscientes de que las transferencias no supone competencias legislativas no hay una relación directa entre una cosa y otra pero también somos muy conscientes y sabemos que la ley se interpreta y se interpreta todos los días y fíjese usted si se interpreta la legislación penitenciaria que la legislación penitenciaria que caben resoluciones para poner en libertad a galindo

caben resoluciones para que pase lo que ayer nos explicó que pasaba en la comisión de derechos humanos la

pero es que además sabemos que se puede hacer circulares

es decir se pueden hacer cosas y se pueden hacer muchas y muy diferentes y cuando me hablaba usted de las penas alternativas yo le voy a recordar todo lo que usted ha dicho y una norma de naciones unidas la ciento diez que pide a los estados que se comprometan en eso

pues que lo haga porque otros estados europeos ya lo están haciendo al partido socialista yo le diría que no entiendo porqué quieren hurtar

no entiendo porqué quieren sacar el debate del parlamento y llevarlo a una comisión fuera del parlamento del gobierno en la que no se sabe muy bien de qué manera vamos a estar ni de qué manera vamos a debatir ni de qué manera lo vamos a hacer

ni nada yo entiendo que el debate hay que hacerlo aquí que hay que hacerlo en el parlamento y que hay que hacerlo en la forma en que hemos señalado porque no es lo mismo un grupo de trabajo que una y no es lo mismo hacer el trabajo conjunto aquí que ir a un sitio donde alguien va a hacer otra cosa y nos la va a presentar y me dice usted es que nosotros tenemos todos los datos sabemos perfectamente cómo hacer las cosas

la política penitenciaria en general y en particular en el estado español y la política penitenciaria del partido socialista en el estado español ha sido negativa ha sido nefasta no ha sido buena

aunque tengan todos los datos coincidirá conmigo en que eso ha sido así y mire ustedes tendrán todos los datos pero la consejera cuando le pregunto cosas me dice no sé no sé

aquí están sus contestaciones no sé de qué datos me habla estas contestaciones están dadas por la consejera con una ampliación del plazo para responder no sabe pero es cuando le pregunto en la comisión tampoco sabe entonces su gestión ha sido cómo ha sido ahora no tienen datos

pues yo creo que es muy complicado dar esta explicación yo no estoy de acuerdo

mire no es lo mismo política de gobierno que política de país

no es lo mismo y nosotras queremos hacer política de país y mire usted a mí me están ustedes diciendo que todo es una cuestión de gobierno y que se van a hacer las cosas rápidamente pues yo le he preguntado a quien tiene que hacer esto

y me ha respondido el día trece de junio diciendo que no se ha producido ninguna reunión sobre la transferencia de prisiones

han pasado cuarenta años desde que se hizo el estatuto más de cien días desde que iniciamos la legislatura es una prioridad

ni una sola reunión para hablar de este tema que es política de gobierno y supongo que también es bilateral

a la ponencia de autogobierno y a la ponencia de paz y convivencia pero vamos a ver

cuál es el objetivo de la ponencia de autogobierno para el pnv no es ir a otro estatus

para que luego el estado nos diga no sé qué cosas a favor o en contra cuando se les presente pero es que estamos hablando de una transferencia que está

desde hace cuarenta años que existe y que se tiene que hacer y se tiene que gestionar y que no es para un nuevo estatus que es para el estatus de ahora es que estamos hablando de cosas diferentes y la ponencia de paz y convivencia

entiendo yo que es para otra cosa porque el planteamiento de nuestra ponencia el global afecta

a todas y en la ponencia de paz y convivencia vamos a tratar el tema

concepción diferente y con un planteamiento distinto y evidentemente está encima de la mesa porque para euskal herria bildu es una prioridad que se derechos amaitzen joan de todos los presos y las presas políticos vascos es una prioridad es una necesidad

es algo que está en la agenda no solamente de euskal herria bildu sino de muchos otros partidos y también de la sociedad pero son cosas distintas claro volvemos a ver otra vez pues el rodillo del teórico tripartito todos de acuerdo

nos preocupa que esto sea una realidad en cualquier caso parece ser que no vamos a hacer la ponencia

el debate a este parlamento euskal herria bildu va a traer propuestas e iniciativas a la comisión de justicia para que esto se haga y vamos a ver

lo vamos a hacer vamos a plantear en los próximos días una batería

comparecencias de diferentes grupos para poder traer aunque ustedes no quieran este debate al parlamento y para poder llevar adelante iniciativas en un tema tan importante

bertatik con su permiso señora presidenta desde el escaño
señora goirizelaia no se trata de que nos neguemos a que esta ponencia se constituya porque haya una

del asunto de la trasferencia de prisiones no es que nos negamos a la constitución de la ponencia o lo no lo consideramos

anteriormente una porque el objeto de la ponencia según ustedes en primer lugar era establecer las condiciones el modo la forma momento y oportunidad

eso no es un objeto de una ponencia sino que eso debe ser

gobiernos que están implicados en la materia y en segundo lugar porque usted me habla de interpretaciones

usted lo que quiere es o pretende o cree que en esa ponencia se pueden plantear cuestiones sobre modificación de legislación penitenciaria

que como le he dicho no es competencia ni va a ser competencia después de la transferencia del gobierno vasco

establecer un nuevo marco penitenciario es algo que excede de esa ponencia y que no puede ser objeto de esa ponencia porque no vamos a debatir o hacer una ponencia sobre cuestiones

que estamos abiertos al debate por supuesto se lo he dicho antes no es ningún impedimento que no exista la ponencia para que como ha existido en legislaturas pasadas

que podamos adquirir y que nos puedan ayudar precisamente a ejercer mejor esas competencias pueden venir propuestas las que se quieran

le había agradecido yo señora goirizelaia en mi primera intervención

a un colectivo global de población reclusa en su segunda intervención ha entrado directamente a lo que realmente subyace en su interés por la transferencia de instituciones penitencias por el debate en política penitenciaria no le voy a entrar sí es cierto que me habían preparado también alguna réplica posible en ese ámbito pero no le voy a entrar mire no le voy a entrar porque el viernes tuvimos la posibilidad de participar durante muchas horas algunos otros un poquito menos y pudimos tomar nota los que

con respecto a cuáles son las propuestas y las necesidades que todas las entidades que están conformadas en la red esen

nos decían y creo que puede ser oportuno porque ellos nos decían y nos dieron un documento que lo tenemos todos que se lo ha dicho el señor zorrilla

que presentan un cúmulo de déficits y necesidades educativas sociales formativas sanitarias económicas administrativas emocionales y que esta la atención a todas estas necesidades de la población reclusa es lo que

aportaría que además de trabajar como estamos trabajando en sanidad educación prevención también podamos hacer una atención personalizada e integral

que queremos la gestión que queremos realizar es una gestión no específica para un colectivo concreto que a usted le interesa más no nosotros estamos hablando

creo que no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo para nada el partido socialista yo creo que tampoco el partido nacionalista ni el partido popular está diciendo en este momento que vayamos a hurtar el debate lo que le estamos diciendo pero usted no quiere escuchar es que el análisis

el gobierno el departamento al que le corresponde la planificación y lo va a hacer precisamente

porque usted me dice hay que escuchar todos los puntos de vista derecho judicatura sociología psicología criminología acción social ética pues esto es lo que se va a hacer en esa mesa de trabajo

que podrá acceder a él y podremos debatir aquí con un análisis realizado por las partes concernidas en este tema

que al propio contenido entonces usted lo ha dicho y tiene razón

la tenemos y nosotros lo que estamos intentando es que se organice un tema de análisis

bueno desde su óptica sí desde su óptica sí es fundamental para el análisis conocer cuántos creo que usted ha preguntado

en qué circunstancias están qué colectivos específicos porque usted me ha hablado de mujeres allí nos hablaron de enfermos mentales nos hablaron de minorías étnicas nos hablaron

de drogadicciones nos hablaron de exclusión social de aislamiento familiar nos hablaron de muchas cuestiones que parece ser que no es lo que

le interesaba resaltar por tanto nosotros

al debate a la proposición y a que acompañemos en el camino creo que he cerrado yo mi intervención diciéndoselo que lo importante es que todos compartamos la filosofía y el objetivo de qué tiene que hacerse con esa transferencia de gestión de políticas

penitenciarias y que lo que tenemos es que abogar

no comparto y lo sabe usted cosas específicas argumentos los tenemos todos con respecto a por qué se hacían unas cosas y qué resultados tenían cuáles fueron las actitudes de unos y cuáles eran las actitudes de otros pero como no le voy a entrar

asociaciones allí presentes que lo importante no era lo que había pasado hasta ahora sino vamos a ver cómo somos capaces de afrontar el futuro le emplazo a que en sus siguientes intervenciones en este campo

barkatu tejeria andrea cuando estaba oyendo a las compañeras parlamentarias explicar cosas difíciles de explicar

es una propuesta lógica es normal hay un problema complejo que tenemos delante como es la trasferencia de prisiones y su gestión y tenemos que ponernos de acuerdo

entonces me recordé el libro de michel foucault muy bonito que recomiendo las palabras y las cosas

cómo nombrar las cosas a veces tienen mucha distancia yo creo que no es necesario inventar palabras y mucho menos plantear argumentos artificiales

problemas en la sociedad problemas en nuestras bases políticas

pero qué va a pasar cuando pongamos centros de inserción social

o en getxo un centro de reinserción social de presos y presas que han salido porque tienen derecho al tercer grado qué va a pasar que nuestras clases medias van a pedir la cabeza de los políticos

o no necesitamos explicar que necesitamos otro modelo

en elkarrekin podemos estamos discutiendo este asunto no tenemos las ideas acabadas estamos discutiendo este asunto leyendo al ararteko leyendo los trabajos de la escuela

si el pp y el pnv quieren negociar entre ellos y evitar molestias y

nosotros creemos que ese no es el problema el problema es que vamos a negociar a gestionar a planificar

este es el problema con otro modelo de reinserción social

diga lo que diga la colega llanos sabemos

cómo la ley penitenciaria se interpreta cómo la sanidad penitenciaria ya se ha trasferido cómo en la misma sala de gobierno del tribunal superior de justicia pidió

para gasteiz es su competencia o no es su competencia no sé si es su competencia pero ya lo ha pedido el tribunal superior de justicia del país vasco

yo creo humildemente y en nuestra organización que estamos muy atentos a las propuestas por ejemplo de bildu por ejemplo de los colectivos de presos

estamos muy atentos yo creo que es muy soberbio tener opiniones muy acabadas sobre estos temas vamos a enfrentar problemas políticos y sociales con la gestión de prisiones

en la sociedad vasca vamos a tener problemas para poner un modelo propio de gestión

laborales de reinserción de presos y presas no solamente tenemos que revisar

con castigos sobreañadidos que no tienen ningún sentido en este momento claro que vamos a tener

a las víctimas siempre hay que oírles pero no deciden las políticas nosotros decidimos las políticas perdón

no participe no apoye el contraste de ideas las discusiones que todos tenemos que tener

los procesos de gestión se interpretan osakidetza es un ejemplo compare usted con madrid o con andalucía eskerrik asko

brevemente decía la señora goirizelaia que es distinto política de gobierno y política de país

ya ha pasado la época en que algunos decían que representaban a la voz de la sociedad vasca entonces yo creo que la legitimación

para llevar a cabo esta labor y en cuanto a los objetivos yo no sé usted puede pensar que son de gobierno yo pienso que son de país el acuerdo de gobierno dice pilares para construir una euskadi con más y mejor empleo más

más convivencia y más y mejor autogobierno si esto cree que es política de gobierno pues allá usted nosotros creemos que es una clara declaración de intenciones de política de país

yo le diría que se ha reclamado en múltiples ocasiones no voy a hacer enumeración ahora aquí pero sí que la comisión mixta dos mil uno dos mil cuatro dos mil seis y dos mil siete le preguntaría dónde estaban ustedes cuando el pnv lo reclamaba en tercer lugar las ponencias que son para otras cosas

lo que se trata es en primer lugar de la defensa y reclamación del autogobierno reconocido para la actualización del pacto estatutario vasco si para ustedes es una prioridad creo que tienen un foro adecuado para plantearlo al igual que en la ponencia de memoria y convivencia

de debates sobre política penitenciaria fraccionada y dividida en distintos ámbitos y finalizaré mi intervención haciéndole dos preguntas que ya sé que no puede responder que son retóricas pero bueno

de volverlas a hacer me las contestará en aquel momento hablan de cataluña que desde mil novecientos ochenta y cuatro tiene esta competencia transferida yo les diría si se han preguntado a la izquierda abertzale por qué en euskadi todavía no la tenemos treinta y ocho años después de la aprobación del estatuto de gernika y en segundo lugar

ahora como siempre llegan treinta y ocho años tarde y encima con prisas y urgencias

que es donde se refleja la soberanía de la sociedad vasca y o en el congreso de los diputados solicitando la transferencia para euskadi besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

para ello lo lógico es empezar por definir a qué nos referimos cuando hablamos de estas dos cosas la exclusión residencial

una manifestación de la exclusión social relacionada con el acceso al bien básico que es la vivienda tiene múltiples definiciones y espacios desde donde acercarse a ella podemos entender que nos referimos al hablar de exclusión residencial a aquella que abarca toda situación individual o familiar en la que no se tienen resueltas las necesidades de alojamiento esta definición abarca una amplitud que implica a las personas abocadas a vivir en situación de dependencia o en condiciones de infravivienda

hay otro tipo de definiciones o planteamientos teóricos que dicen que no se puede aislar la exclusión residencial de la exclusión social y por lo tanto son fenómenos que van de la mano en euskadi la definición más consensuada y que se utiliza tanto por el tercer sector impulsor sin parangón del trabajo

con personas sin hogar como el que se utiliza las instituciones

y que se conoce como definición ethos una definición que pretende establecer un lenguaje común para poder emprender procesos consensuados de trabajo esta definición hace referencia a cuatro tipologías

inadecuada es importante señalar que dentro de las diferentes definiciones se contemplan diferentes situaciones por ejemplo dentro de vivienda

legal sin un contrato de arrendamiento con

por otro lado cuando hablamos de empadronamiento hablamos del registro donde figuran todas las vecinas o vecinos que viven

según la ley de bases de régimen local que regula este registro toda persona que viva en el estado tiene la obligación de empadronarse en el municipio que resida y dicho esto voy al motivo de la iniciativa planteábamos en la justificación de la misma que en euskadi hay dos mil trescientos personas en situación de exclusión residencial

en aquellas que se encuentran en la parte más vulnerable de las categorías que son las personas sin hogar en este sentido hoy tenemos una oportunidad de visibilizar

con hombres en situación de calle por ejemplo el último informe sobre exclusión residencial nos pone en relevancia la perspectiva de género ya que revela por ejemplo entre otros el perfil de

en las mujeres esta es una de las cuestiones que podemos encontrar mujeres en situación

mujeres que despliegan estrategias para evitar la calle o utilizan recursos residenciales esta es una de las situaciones pero existen otras sabemos que las administraciones vascas han dado pasos importantes en esta materia

para abordar las problemáticas de las personas sin hogar y sabemos también que se va a poner en marcha en breve una estrategia vasca de personas sin hogar

y de hecho estamos dispuestas como siempre a aportar en lo que podamos y en lo que tengamos cabida sabemos también que desde julio del año dos mil dieciséis existe un protocolo de colaboración institucional

también aplaudimos y también estamos dispuestas como siempre a aportar en lo que podamos y en lo que tengamos cabida

que dentro de los múltiples factores que afectan a la exclusión residencial hay un elemento clave que es el empadronamiento porque el empadronamiento es una llave de acceso a los derechos al derecho a la educación al derecho a la salud al derecho a la vivienda al derecho a la garantía de ingresos

y es por eso que hoy venimos aquí a presentar una proposición asentada en tres ideas por un lado la necesidad de abordar la exclusión residencial más allá del sinhogarismo con todos los elementos institucionales implicados

por el gobierno como agente entendemos esencial a la hora de liderar

estos temas y tomando como referencia que es desde el gobierno desde donde parte la estrategia de personas sin hogar entendemos que esta estrategia de personas sin hogar es una pata fundamental para este trabajo entendemos que además

de los cuales yo desconocía en el momento de presentar la moción la necesidad de realizar un diagnóstico es otra de las ideas sobre las que asentamos

con una mirada amplia siempre sobre la exclusión residencial entendiendo que el acceso al empadronamiento posibilita o frena el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y que es un elemento fundamental a tener en cuenta

incorporar este diagnóstico a la estrategia vasca de personas sin hogar como no puede ser de otra manera porque entendemos que es la herramienta de trabajo fundamental que en esta estrategia se contemple además una mirada técnica sobre el empadronamiento y las problemáticas de acceso porque no tener una vivienda es un drama tener vulneración de derechos es un drama para muchas personas

a veces es mucho más importante que no tener una vivienda o por lo menos tan importante como porque supone trabas en el ejercicio de derechos de la ciudadanía entendemos

es importante dar un paso más de los ya dados hasta ahora en el abordaje de problemáticas que tienen que ver con la inclusión social es importante conocer cuáles son las dificultades que encuentra la ciudadanía

de las bases del régimen local todas las personas insisto todas deben estar empadronadas en el municipio de residencia habitual sabemos que no es competencia de este parlamento determinar lo que hagan o dejen de hacer los municipios pero sí que en esta estrategia los ayuntamientos están incluidos y el gobierno lidera sabemos además también

de la dirección general de coordinación de competencias con las comunidades autónomas y entidades locales se establece que la inscripción en el empadronamiento ha de ser independiente de las controversias jurídico privadas sobre la titularidad de la vivienda

la ausencia total de techo como una de las situaciones que pueden darse pero no la única sabemos también que hay municipios que han emprendido iniciativas para poner en marcha padrón ficticio padrón social sabemos que esto es una solución pero también sabemos que esto no se da en la totalidad de los territorios

además entendemos que este trabajo que hoy proponemos y acordamos puede ayudar por un lado a saber cuántas personas viven aquí pero no constan para nadie el protocolo interinstitucional afirma que hay un déficit de estadísticas y estudios específicos que recopilen datos sobre la incidencia y las características socio demográficas del colectivo de personas sin hogar

se están diagnosticando las dificultades existentes en este ámbito pero no se aborda o no se aborda en la magnitud que entendemos que sería necesario los problemas de acceso al empadronamiento que entendemos que además contribuiría a subsanar

el protocolo además creemos que es importante y que esto puede ayudar a dejar constancia de las consecuencias que para muchas personas tiene es impedimento de acceso al padrón y además entendemos que las personas que conforma la comisión

y entendemos también y por último que hoy estamos dando un pequeño paso

de esas dificultades de acceso a los derechos y desde ahí me toca agradecer como no puede ser de otra manera la generosidad de quienes hoy han hecho un esfuerzo para encontrar acuerdos creo que este es un buen acuerdo ya he dicho en una de mis primeras intervenciones en esta tribuna que en materia de políticas sociales nos toca buscar acuerdos no sacar

entendemos que toca mejorar lo que existe con una mirada larga con paso corto con ganas y con soluciones creativas participadas en las que todas las personas tengamos cabida y en la que desde luego el horizonte sea mejorar las condiciones de las personas

hoy estamos hablando en este punto de exclusión residencial la fuerte contracción del mercado inmobiliario como consecuencia de la crisis del sector de la construcción los ajustes en el sector financiero el sobreendeudamiento hipotecario del pasado el nivel de paro y el aumento de la precariedad laboral

incrementado el riesgo de exclusión residencial grave para los ciudadanos en euskadi los socialistas conscientes de este deterioro comenzamos a afrontar esta cuestión de raíz y lo hicimos desde el gobierno vasco impulsando medidas de mediación que impidiesen desahucios y que ha sido ejemplo para otras ciudades y municipios y comunidades pero también comenzando desde el gobierno dirigido por patxi lópez y culminándolo

fuimos capaces de consensuar una ley de vivienda que garantizaba el derecho subjetivo que solo en el pasado año el primero de su aplicación permitió a seiscientos familias disponer de un techo del que carecían y que en este año

a través del correspondiente decreto pero con todo incluso

como un derecho esencial sobre el que construir el resto de los derechos hay distintas razones por las que se mantienen demasiadas personas en un riesgo grave de exclusión residencial según datos disponibles

el número de personas en situación de exclusión residencial grave en nuestra comunidad autónoma

en las calles de los municipios vascos los poderes públicos deben ser capaces de reaccionar con diferentes niveles de medidas sociales económicas y asistenciales

estas situaciones de emergencia social provocadas de dramas humanos derivados de múltiples causas y que están afectando a una parte de nuestra sociedad dando lugar al sinhogarismo y a la exclusión residencial por no poder acceder de una forma permanente a un lugar adecuado de vivir

el actual sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión social en la doble dirección no solamente de garantizar los ingresos mínimos para toda la ciudadanía sino también en la puesta en marcha de políticas de inclusión efectivas es importante garantizar de manera efectiva el acceso universal e igualitario a los servicios públicos especialmente para las personas más vulnerables pueda producirse ningún tipo de discriminación en el acceso y en plena igualdad de oportunidades dentro del acuerdo del gobierno firmado por el gobierno

se señala que uno de los objetivos en esta legislatura es la de consolidar también el sistema vasco de servicios sociales le damos importancia a ello y nuestro sistema garantiza la atención de las necesidades de las personas

y para ello contamos con el desarrollo de carteras de prestaciones de servicios el plan estratégico de servicios sociales dos mil dieciséis dos mil diecinueve el plan de inclusión social el protocolo de colaboración interinstitucional para la investigación seguimiento y análisis

firmado en julio del dos mil dieciséis y estamos a punto de contar con la estrategia vasca de personas sin hogar dos mil diecisiete y dos mil veinte que nosotros deseamos

y dentro de esta estrategia hay un compromiso de contar con la participación del tercer sector social creo que contamos con muchas herramientas en estos momentos por lo que los socialistas vascos consideramos que no era necesaria la creación de una nueva comisión

entre ayuntamientos diputaciones gobierno vasco y ararteko tal como estaba planteada en la iniciativa original del grupo elkarrekin podemos el protocolo existente ya lo es de colaboración interinstitucional para la investigación seguimiento

residencial grave en nuestra comunidad autónoma vasca no se necesita nada más en estos momentos ya que desde el año dos mil doce se viene trabajando de forma coordinada en la investigación y análisis

históricos los ayuntamientos de bilbao donostia san sebastián y vitoria gasteiz y las asociaciones de municipios y provincias vascos y eudel pudiendo ser suscrito por todos los

participar y consecuencia de esa colaboración se han realizado ya dos informes conjuntos sobre la situación de exclusión residencial en la comunidad autónoma del país vasco uno en el año dos mil trece y otro en el año dos mil quince

en el que insisto ya existe esa colaboración interinstitucional tiene como finalidad la de dotarse un marco estable a este tipo de iniciativas

interinstitucional de atención a las personas sin hogar en euskadi se han venido realizando en los últimos años como bien han señalado también

representantes de otros partidos que me han hablado antes

en los últimos años ha venido realizando recuentos de esos censos de personas en situación de exclusión residencial grave tomando como referencia la metodología o tipología europea

de nivel europeo para la definición sistematización y clasificación de la exclusión residencial el último se ha efectuado en el dos mil dieciséis y los recuentos se efectúan como marca este protocolo cada además en el año sucesivo de hacer el recuento se elabora el informe de los resultados del mismo y por tanto también ese informe se tiene que realizar

la elaboración por parte del gobierno vasco este protocolo además crea una comisión técnica interinstitucional para su seguimiento es por ello por lo que considera más coherente la enmienda transaccional

original y esa enmienda hemos hecho como bien ha señalado la señora guanche un importante esfuerzo todos los diferentes grupos

para llegar al acuerdo que hoy vamos a aprobar y que donde se encarga a la comisión técnica

en la estrategia de atención a las personas sin hogar en la comunidad autónoma vasca que analice a fondo las necesidades de las personas en situación de exclusión residencia en relación a su acceso de empadronamiento y una vez efectuado realice las recomendaciones que estime oportunas y además esas recomendaciones

vasca de personas sin hogar dos mil diecisiete y dos mil veinte y también destaca la importancia y el valor que tiene el protocolo que actualmente

ya desde luego el empadronamiento es la puerta principal de acceso al sistema de protección social pero no es la única porque como bien ha señalado la señora guanche

de españa donde da una serie de instrucciones técnicas a los ayuntamientos y donde señala que no ha dicho la señora guanche la referencia a las personas

dentro de los casos especiales de empadronamiento para casos de infraviviendas o casos de personas sin techo y además habla de lo que se considera domicilio ficticio para las personas sin techo

de elaboración de un informe por parte de esos servicios sociales pudiendo marcar como empadronamiento el domicilio que esos servicios sociales puedan considerar conveniente

del empadronamiento dentro de esas recomendaciones dentro de la estrategia vasca de personas sin hogar dos mil diecisiete dos mil veinte nos parece buena y es por ello por lo que mi grupo a votar por supuesto a favor de la enmienda transaccional que hoy vamos a aprobar porque tiene en cuenta el trabajo que ya se está realizando en la materia evita duplicidades e incorpora el estudio de referencia de empadronamiento
para ser tenido en cuenta nada más y muchas gracias eskerrik asko euzko abertzaleak arregi andrea

no se exige empadronamiento para el servicio de atención diurna para personas en situación de exclusión

ni para acceder a los centros de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social servicios todos ellos contemplados en la cartera de servicios sociales

que es importante traer a colación estos datos para poder entender la problemática que nos ocupa en su justa medida

original parece desprenderse que las personas sin hogar y en situación de exclusión social

ellas se encuentran sin empadronar eta hori ez da datuek esaten dutena asimismo es importante conocer en cifras los datos básicos

de la situación y servicios que nuestras instituciones junto al tercer sector prestan existen dos mil setecientos setenta y uno plazas de alojamiento mil quinientos cincuenta y cinco plazas de centros de día

y casi mil voluntarios lo cual suponen cuarenta y cinco millónes de euros anuales de los que el ochenta y seis por ciento son financiados por las administraciones públicas

suponen una clarificación de todo lo que tiene que ver con la garantía del derecho subjetivo a los servicios sociales para las personas

son las que están en situación de exclusión residencial grave como bien saben las tres diputaciones forales y los ayuntamientos están trabajando

a la exclusión social todo ello constituye avances importantes gure erakundeak arduratuta eta okupatuta daude etxebizitzarik gabe

pasa den urrian egin zelarik bi mila hamaseiko urrian el martes pasado también se aprobó en el consejo de gobierno

hogar dos mil dieciséis en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de euskadi la encuesta

restauración u otros tipos de servicios a las personas sin hogar gratuitamente o mediante pago de una pequeña cantidad

es conocer las características de los centros tales como prestaciones ofrecidas población atendida fuentes de financiación

es cierto que las instituciones de euskadi están trabajando por mejorar la situación y atención a este colectivo son conscientes y comparten con el tercer sector la necesidad de ir más allá de la cartera de servicios sociales y de establecer un marco estratégico

a esta cuestión existe el compromiso del departamento de empleo y políticas sociales de elaborar una estrategia vasca contra la exclusión residencial grave

y que está bastante avanzada para ello cuenta ya

en el que se analiza la situación de estas personas y se realiza una comparativa con otros estados europeos como también se ha dicho un grupo interinstitucional está trabajando y avanzando en relación al diagnóstico presentado así como las características básicas y los contenidos de la misma

también se ha contado con la opinión y punto de vista de diversos agentes sociales y varias organizaciones del tercer sector

heldu gara talde proposatzailea eta zuzenketak aurkeztu ditugun taldeok una transaccional que supone una continuación

del protocolo interinstitucional firmado hace casi un año y cuyos trabajos animamos a continuar instituzioak eta eragile sozialak ziur gaude

resaltar que de forma específica y dentro de la estrategia que el gobierno vasco está ultimando hay una directriz que se refiere a la garantía de acceso a las personas sin hogar a los derechos de ciudadanía mediante la regularización de su situación que va a ser objeto de desarrollo yo creo que dentro de esa directriz tendrá cabida la problemática relacionada con el empadronamiento que evidentemente es importante y por eso

gracias señora presidenta señores consejeros y miembros de la cámara presente buenos días a todos y buenos días especialmente a la señora guanche que nos ha traído esta iniciativa

ilimitada señora guanche me parece muy loable el objetivo

en situación de exclusión residencial que necesitan que nos preocupemos por ellos a partir de ahí pocas palabras buenas puedo decir de su iniciativa porque creo que el análisis de la causa de que esas personas se encuentren en esa situación es muy simple y usted fundamentación de la iniciativa y en el discurso que nos ha hecho hoy aquí pone la causa de que esas personas se encuentren

los más potentes de europa que son los que las administraciones vascas prestan a sus ciudadanos en el hecho de que no pueden estar empadronadas o que no pueden acceder

no son sujetos de esos derechos que nuestra ley de servicios sociales otorga a las personas residentes en la comunidad autónoma de euskadi y eso no es cierto usted sabe perfectamente que la legislación amplía a esas personas para que puedan acceder al padrón usted sabe que las personas transeúntes que son aquellas que no tienen una residencia fija

a los itinerarios y a las ayudas que prestan tanto las diputaciones como los ayuntamientos por lo tanto la causa de que esas personas

al sistema de protección social que tenemos no es la ausencia de empadronamiento en general esa es la causa por la que usted centraba el debate pero luego en las propuestas de resolución que nos hacía

no atinaba tampoco en ninguna solución porque realmente

pero no les ofrecía ningún tipo de solución clara más allá de que se inste al gobierno a que cree una comisión que ya existe por cierto

el empadronamiento de estas personas que viven en una situación muy difícil

muy diversas y muy diferentes por eso decidimos no enmendar en absoluto su proposición no de ley y vamos a rechazarla y votar en contra porque entendimos que la causa a la que usted otorgaba esos males de esas personas y las soluciones que proponía

de nada pero le digo que genera en mí perplejidad porque el acuerdo

con el resto de los grupos enmendantes de su proposición no de ley tampoco propone ninguna solución es decir usted nos trae el foco sobre un problema existente y las soluciones que nos propone no son ninguna únicamente dice que se continúe haciendo lo que ya se está haciendo por lo tanto entiendo que

es completamente estéril no hemos solucionado nada a estas personas que viven en esa situación de exclusión residencial ni vamos a poner fin a los problemas que eso conlleva para ellos y para sus familias los tres puntos del acuerdo lo único que vienen a decir con cierta falta de entusiasmo por cierto es que el gobierno continúe trabajando en la línea de lo que ya ha estado haciendo es decir que

unos buenos objetivos y que la comisión que ya viene funcionando pues continúe en las mismas condiciones pues para eso en vez de que elkarrekin podemos nos traiga este tipo de proposiciones no de ley que lo hagan los partidos que sustentan al gobierno que ya han bajado a defender lo bien que lo está haciendo el gobierno en este asunto es que ni siquiera

en la actuación del gobierno yo pensaba que esta proposición no de ley era una proposición no de ley de exigencia al gobierno o de control del gobierno

obviamente el acuerdo lo vamos a suscribir también desde nuestro grupo porque no dice nada malo dice que se continúe trabajando en esa línea y veremos en esa estrategia dos mil diecisiete dos mil veinte cuando llegue a esta cámara cuando se nos explique pues qué soluciones

realmente para un colectivo de personas que insisto usted creo que con buena intención nos ha traído hoy a discutir a debatir pero desde luego no a proponer ninguna solución a los problemas que les han llevado a esa situación muchas gracias

y puedo hacerme entender mejor lamento generarle perplejidad

no he dicho no pretendía decir que la falta de empadronamiento sea la causa

intentaba hacer el discurso y tal vez pueda haberse entendido mal he dicho específicamente que las personas sin hogar están en

precisamente por múltiples factores y por unos problemas que tienen un montón de dimensiones

que el único problema que tengan es el empadronamiento en cualquiera de los casos tampoco tengo la soberbia de pensar que soy yo quien tiene que plantear soluciones a una problemática que es extensa que se viene trabajando desde múltiples ámbitos y desde luego en la que no tenemos competencia cuál ha sido la intención más o menos acertada más o menos buenista de traer esta iniciativa hoy a este parlamento desde luego

que es importante y que desde luego genera problemáticas que no están resueltas señora arregi coincido con usted y me alegro un montón de que el ochenta y cinco por ciento de las personas en situación de exclusión residencial estén pero hay un quince por ciento que no está

como sea necesario creo que eso es para todas creo que la intención de la iniciativa tenía que ver con eso y creo que lo que tenemos que celebrar

llegado a este acuerdo que a mí no me parece vacío no sé si soy mucho o

no creo que sea demasiado pero sí que soy una persona a la que le preocupan este tipo de problemáticas que en general bueno pues se ven menos o resultan menos de bombo y platillo

en que esta iniciativa no aporte nada esta iniciativa aporta el seguir

reconocerlo pero además ampliar un ámbito de actuación que no está reconocido en el protocolo

el resto no tenemos sí que está contemplado pero en el protocolo que está firmado en julio de dos mil dieciséis

el empadronamiento solamente se nombra o se pretende regular de alguna manera los estudios y los trabajos de recuento que se vienen haciendo años cosa que insisto aplaudo y me parece que es una iniciativa muy interesante ya llevamos unos cuanto años recontando

ahora tenemos que buscar soluciones lo que viene esta iniciativa a proponer es que dentro de esa búsqueda de soluciones

para las personas en situación de sinhogarismo pero en general insisto para las personas que se encuentran

mucho más amplio que la mera situación de calle

hablar de estas personas y de estas problemáticas en este marco y en este pleno e insisto

el reconocimiento absoluto al trabajo que está bien hecho desde el reconocimiento absoluto a los mecanismos que están creados que yo insisto desconocía la existencia de una comisión técnica mixta

que está todavía en el horno como quien dice sabiendo que existe no voy a mantenerme por llevar adelante mi iniciativa pura y exclusiva en que se cree un elemento que ya existe entonces lo suyo es aprovechar los espacios de trabajo que hay y desde luego no bajar

y parece ser que hoy también demostramos que hay voluntad política para hacerlo

es lo suficientemente importante como para que estemos hoy aquí trabajando por mejorar que eso deje de pasar mila esker

de protección pero es verdad que todos esos derechos si no se pueden ejercer

que queda en un segundo plano porque no es verdad señor arbulo

puedan acceder a esos itinerarios no es verdad y si no puede revisar usted los requisitos que las diputaciones forales y algunos ayuntamientos tienen para acceder a los recursos destinados a los itinerarios

para hacer procesos de inserción lo puede revisar porque como decía la señora arregi hay algunos de esos recursos que no piden empadronado en el municipio pero otros muchos sí y por ejemplo para hacer procesos de inserción

o los recursos que atienden a personas cronificadas sí requieren estar empadronados en el territorio histórico o

usted hacía aquí y por otro lado la señora arregi nos decía

cualquier institución que tenga como voluntad esa voluntad que se ha firmado en el protocolo y que aparece también en las diferentes estrategias de abordar una estrategia

tendrá que plantear aquellos elementos que son básicos

uno de ellos que no el único es el tema del padrón y no es porque nosotros hayamos bajado aquí a decirlo

marcadas por el padrón y lo dice una recomendación del ararteko en la misma línea que dice claramente que

que indica cómo se tiene que establecer los procedimientos de empadronamiento y por otro lado está

y hay ayuntamientos que cumplen estrictamente la ley y que facilitan

y hay otros que no y los datos están ahí también y lo demuestran

en la última encuesta de este último conteo que se hizo en calle

entre las personas que fueron detectadas en calle solamente una de cada tres era perceptora de las prestaciones del sistema de protección solamente una de cada tres y eso tiene sus consecuencias

y eso también tiene sus consecuencias en las condiciones de vida de esas personas con lo cual yo creo que sí es un tema que además ya se ha manifestado que hay una voluntad de abordar y que hay que abordar

de que el proceso que se ha hecho hasta ahora ha sido muy tímido por decir algo

porque bueno yo creo y lo he dicho antes en plural que este no ha sido un tema que sea de primera envergadura en las agendas políticas y en eso yo creo que hay que actuar con cierta honestidad y hay que reconocer que dentro de todos los elementos

de nuestras políticas por eso a mí me parece muy importante ese acuerdo ese protocolo de colaboración y además como lo viví de cerca y sé lo que costó

que había que ponerlo en valor y que es un foro ideal por la constitución por quienes están

en ese foro para trabajar esa problemática porque son muy conscientes de lo que está pero no es una iniciativa que dice

no lo está abordando lo que plantea es que se vaya un poquito más allá y desde luego nosotros lo que planteábamos aquí es que se sigan las orientaciones del ararteko y que

se redacten protocolos que permitan de manera homogénea que este tema del padrón sea resuelto para que así las personas en igualdad de oportunidades puedan acceder a todos esos elementos del sistema de protección que aquí se han planteado

el tema está suficientemente claro creo que se ha hecho un esfuerzo importante en la enmienda transaccional que recoge

el tema del empadronamiento dentro de la estrategia vasca de personas sin hogar dos mil diecisiete dos mil veinte que está a punto de finalizar y que será próximamente presentado y yo creo que

realizándose desde el protocolo y años antes en todo el tema de recuentos y de informes para

grave bueno creo que se da un paso más y por eso nosotros hemos hecho ese esfuerzo de firmar esa enmienda transaccional y es lo que vamos a votar a favor

ya sé que si el ochenta y cinco por ciento están empadronados el quince por ciento no lo están pero lo he explicado y lo he dicho que era porque

se podía desprender que todas las personas en exclusión residencial

que para poder entender la situación había que dar los datos que son los que resultan del último recuento realizado

al grupo popular es un punto que se ha debatido más veces que se ha debatido más veces pero no nos queda más remedio que traerlo de nuevo porque muchas veces

décimos que queremos atraer talento al país vasco

trabajadores de todo tipo porque todos sabemos que tenemos

y señores es por eso que traemos de nuevo el tema

de la materia de euskera hay un documento que se llama el documento de bases para la política lingüística de principios del siglo veintiuno

que les quiero recordar les quiero recordar una frase que sale en él no

es positivo ni adecuado ni criticar determinadas actuaciones en el campo del euskera es necesariamente negativo ni inaceptable

parece que intentar mejorar la convivencia del euskera con la sociedad es un sacrilegio porque parece que ciertos grupos

al rango de religión y lo siento mucho nosotros no nos vamos a achantar y vamos a seguir trayendo a esta cámara temas

en los que creemos que la política hacia el euskera no es adecuada

no puede hacer sufrir a nadie nadie debiera derramar ni una sola lágrima por culpa del euskera

hace sufrir a alguien sí esa persona estará siendo dañada pero principalmente estará siendo dañado el euskera

lema de aek que yo creo que hizo tanto daño al euskera

euskaraz eta kito lo recuerdan ustedes en euskera y se acabó

y para que el euskera prevalezca entre nosotros como algo amado es necesario que nadie derrame una lágrima por él y señores hay gente que sufren con el euskera principalmente sufre con el euskera

que viene a vivir entre nosotros y que viene con imaginemos queremos traer

pero ya digo cualquier trabajador o trabajadora se supone que es bienvenido en el país vasco

y tienen hijos digamos de doce trece o catorce años bueno a esas personas

les hace sufrir les voy a poner el ejemplo claro que traemos hoy aquí llega una persona con un niño que está por ejemplo en segundo eso y qué dice el decreto de las exenciones

que ese niño tiene que estudiar euskera hasta ahí

durante dos años y esa no evaluación durante dos años se puede prolongar a cuatro entonces claro esa criatura que llega en segundo de la eso estudia euskera en segundo en tercero

empieza el bachiller y estudia en euskera el primero de bachiller pero a partir de ese momento

estudia euskera sino que es evaluado llega a la prueba de selectividad y tiene que evaluarse en euskera y eso qué supone que ve amenaza su nota media

me dirán bueno cuatro años es suficiente para hablar en un idioma

se lo digo por experiencia uno va a estados unidos o a inglaterra y pasa un año y puede hablar inglés pero seamos realistas ese niño

la va a hacer en castellano su vida familiar la va a hacer en castellano su vida de ocio viendo la televisión y viendo el cine lo va a hacer en castellano y un idioma tan complejo como el euskera

en cuatro años cuando está restringido al área de enseñanza como para poderse evaluar de euskera o en euskera

eso está pasando he estado leyendo las distintas intervenciones y me voy a dirigir ahora al grupo socialista la señora celaá decía que precisamente eso estaba pasando y cambió el decreto

pequeño apartado en el que la exención podría ser mayor pero ese decreto se actualiza todos los años por medio de resoluciones de la consejería

para este año es que si uno se incorpora en primero

va a tener que examinarse de euskera en el bachillerato y va a tener que hacerlo

en la prueba general para acceder a la universidad que ha pasado por

y qué está sucediendo también gente que el último año se matricula en castro gente que el último año se matricula en logroño los de la zona de

esa gente sufre y si hay algo que necesitamos en el país vasco

al euskera no pretenderán que el grado de masoquismo

tengan afecto por el euskera y ellos lo cuentan y entonces me imagino

o un excelente médico o un excelente catedrático que tienen hijos o hijas de doce trece catorce años

y tiene que elegir entre venir al país vasco o ir a otra comunidad autónoma incluso a otro país

porque es someterles a mis hijos a un estrés extra y el hecho de que esto es verdad es señores que la población no crece

el primer dato que tenemos la población no crece

muy poquito entonces lo que nosotros pedimos aquí es que esa exención de evaluación se prolongue he mirado las enmiendas que han presentado ustedes

ponen paños calientes la de podemos me ha parecido la de elkarrekin podemos barkatu me ha parecido bastante adecuada

me ha dado miedo la de euskal herria bildu y les voy a decir por qué saben lo que dice en el segundo punto no no señora ubera

barkatu pone que hay que garantizar que el euskera será la lengua habitual en las relaciones entre alumnas y alumnos al terminar la eso entonces

si alguien pide señora ubera desde luego esta enmienda yo la he leído puede ser que

si ustedes piden garantizar que el euskera sea

habitual entre alumnos y alumnas saben ustedes iguales que quién son

cómo va a garantizar el gobierno vasco que el euskera sea la lengua habitual entre alumnos y alumnas al terminar la enseñanza iguales iguales

entonces señores yo les pido que reflexionen que reflexionen sabiendo que el euskera no puede hacer sufrir a nadie

alguien no solo sufre esa persona sufre el mismo euskera y por ello por favor les pido una postura receptiva que

será bueno para las personas afectadas y será bueno también para las personas que tienen como proyecto venir a habitar entre nosotros muchas gracias

primero un apunte el único grupo que hemos presentado enmienda

el sentido era absolutamente contrario a lo que la propuesta del partido popular presentaba aquí pero bueno yo ahora lo explico durante el discurso una vez más

pese a alejarse de las preocupaciones de la mayor parte por no decir de la totalidad de la ciudadanía de euskadi otra vez tenemos que debatir sobre nuestra lengua el euskera

para que el partido popular pueda hacer propaganda de consumo interno

de conflicto donde no lo hay otra vez el enésimo intento de confundir a las ciudadanas con debates estériles y otra vez ya se lo anticipo señora bengoechea nos va a tener en frente en la defensa del euskera nuestra lengua propia

cuya tarea formativa en favor de la normalización del euskera

egoera mugagabean exención de evaluación y la palabra indefinida han sido los dos conceptos que nos han llamado especialmente la atención de esta iniciativa

por supuesto a presentar una enmienda a la totalidad alde batetik elkarrekin podemosen ustea da ikasteko erarik hoberena

sin embargo somos conscientes de la existencia de casos que requieren un tratamiento más diferenciado incluyendo la exención del euskera en este sentido

con el objetivo de mejorar el acercamiento del euskera al alumnado porque realmente se soluciona el problema solo a través de modificaciones en esta normativa

niños y niñas que no aprenden el euskera en cuatro años la normativa y lo más importante aún que estas personas

en euskera creen ustedes que depende de la modificación de una normativa dicho de otro modo nos interesa que el alumnado aprenda euskera se comunique en euskera y viva en euskera o nos interesa que el alumnado

la normativa vigente ya establece que aquellos estudiantes que se incorporen a cualquier colegio de euskadi procedentes de otros sistemas educativos estarán exentos de la evaluación del euskera durante dos años prorrogable de forma excepcional hasta un máximo de cuatro años

pues bien veamos cuáles son estos casos y comprobemos si el problema se soluciona con una flexibilización mayor de la normativa en casos extremos

en recursos en política lingüística para que el alumnado que necesita más apoyo en euskera disponga de él hau esanda arazoa bada ume guztiak lau urteetan

sin duda alguna es responsabilidad de todos y todas las aquí presentes mantenernos firmes ante la defensa del euskera y ello pasa por apoyar al alumnado en su aprendizaje

porque los derechos lingüísticos y la convivencia de las dos lenguas oficiales

donde se trató este tema bien en cualquier caso yendo a lo que nos ocupa

son la excepción a la regla los casos son escasos afortunadamente pero existen es cierto lo que no se puede dar es ninguno de los dos extremos

a miranda de ebro o a castro mal dicho y mal hecho pero si algún alumno o alumna por su origen se niega a ser escolarizado a recibir enseñanza en euskera

el estatuto de autonomía de euskadi establece en su artículo seis que el euskera lengua propia del pueblo vasco tiene el carácter de lengua oficial en la comunidad autónoma junto con el castellano

ambas lenguas hay que dar soluciones específicas a la casuística específica que se plantee

decían que todo niño o niña que ya llegara a primaria estaba exento

y a partir de entonces la política lingüística ha venido evolucionando el texto nuevo que se introdujo de la disposición final segunda de ese decreto dice así de acuerdo con lo establecido en la ley diez barra mil novecientos ochenta y dos de veinticuatro de noviembre básica de normalización del euskera

que hayan iniciado sus estudios en un sistema educativo que no incluya el área o materia de lengua vasca y literatura o que justifique debidamente su residencia no habitual en la comunidad autónoma del país vasco podrá ser eximido de la enseñanza o evaluación

porque no queremos que nadie sea eximido de la enseñanza salvo casos excepcionales como pasar aquí seis meses o un año o llegar aquí en primero de bachillerato

y otra muy distinta es ser eximido de la evaluación durante un determinado tiempo

fomentar que el alumno estuviera en la enseñanza del euskera de la enseñanza de la lengua vasca y literatura en los términos que determine el departamento de educación en todo caso en dicha regulación que buscará que el mayor número de alumnos siga la enseñanza del euskera se tendrá en cuenta entre otros factores

su historial académico y las características sociolingüísticas del entorno eso ya lo recoge

por lo tanto la ponderación fue norma y hay un límite y es que efectivamente esa persona pueda estar en riesgo de no poder seguir sus estudios y ahí es donde se encienden las alarmas pero tenemos que confiar en que el sistema educativo que está en manos de profesionales ahora bien este hecho no implica

que tiene que trabajar con o en dos lenguas cooficiales quede automáticamente eximido

hay que ir acompañándolo con planes individualizados porque para eso están los profesores de refuerzo lingüístico y para eso están también los servicios educativos la inspección educativa

para ello también tenemos la ponderación lingüística tenemos a niños de cuatro años que han venido hace dos y hablan perfectamente el euskera

en la que no se habla tanto el euskera ciertamente va a necesitar mucho más respaldo y más apoyo en la escuela pero tampoco la escuela puede hacerlo todo

la escuela es crucial pero no puede hacerlo todo no debe y hasta ahora la escuela ha venido haciéndolo todo o casi todo

y formalizándose con el habla y con el uso y es por eso que opinamos que la escuela

porque es verdad que la escuela formaliza el pensamiento y por lo tanto requiere del lenguaje pero el fin de la educación no es solo el conocimiento lingüístico la lengua es fundamental

y la lengua configura también el pensamiento pero ciertamente no puede ser el único objetivo el de la lengua el de enseñarnos lenguas por lo tanto al igual que defendimos en su momento lo volvemos a hacer ahora

ponderaciones y esa posibilidad de ponderar existe en el decreto de tal manera que se enciendan las alarmas cuando existen casos que realmente deriven en una exención puntual pero la normativa tal y como está a no ser que se aplicase de manera desmesurada creo que nos vale

automáticamente estaría exento y yo creo que no porque si entra en primero de la eso tiene seis años por delante para aprender una lengua y más a esas edades porque claro que no es lo mismo entrar en primero de la eso o en cuarto de la eso por eso es importante la ponderación

los servicios educativos lo que sería denunciable es que un alumno o alumna vaya a una ventanilla

eso sería denunciable evidentemente habría que coger al niño o a la niña ver sus peculiaridades

y atenderla conforme a sus necesidades lo que no se puede tolerar es que sencillamente

a las clases de euskera y por qué no si además se le permite que no sea evaluado hasta que no adquiera un nivel razonable porque eso también está recogido en la normativa actual

pero sin permitir que aquellos que se quieran escapar de la normativa por los márgenes se puedan escapar sin justificación adecuada porque también existen alumnos y alumnas

porque su entorno no es euskaldun pero no por ello están exentos de evaluarse o alguien que esté de paso y luego quien sabe cuándo volverá a estar en este país la configuración del sistema educativo vasco tiene sus características especiales es verdad es un sistema bilingüe

lo que hay que hacer en eso le doy la razón es controlar y cuidar

de forma eficiente y de forma razonable y justa de forma que no sea causante de males mayores y por lo tanto creo que con lo que he dicho hasta ahora señora bengoechea

su iniciativa eskerrik asko pastor jauna

señora bengoechea efectivamente no todo vale para hacer a favor del euskera como no todo vale para traer cualquier cosa

contrastado y bien analizado dice euskera desde el amor estamos de acuerdo pero solo con amor no se consiguen las cosas

como dice la canción quiéreme menos y háblame más

la disposición adicional trigesimooctava que esa ley incorpora a

las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano lengua oficial del estado

y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas

al finalizar la educación básica todos los alumnos y alumnas deberán comprender y expresarse de forma oral y por escrito en la lengua castellana y en su caso en la legua cooficial correspondiente tres

adoptarán las medidas oportunas a fin de que la utilización en la enseñanza de la lengua castellana o de las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho

las administraciones educativas deberán garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en ambas lenguas oficiales y en la nueva disposición

la asignatura lengua cooficial y literatura deberá ser evaluada y se tendrá en cuenta en la misma proporción que la asignatura

un plan de trabajo individual con cada alumno es lo que tenía que hacer la escuela

para que luego se pueda incorporar al nivel que exige el currículum orduan zuk bengoechea andrea zer nahi duzu

beraz zertarako ekarri duzu proposamena hona y desde todo el respeto del mundo se lo digo

haya que considerar que los principios más elementales en los que se asienta nuestra existencia como país puedan ser removidos de esta manera tan burda y provocadora

sigue siendo un estorbo del que se puede prescindir porque contesteme también va a proponer que a un alumno o a una alumna de lengua materna francesa chica o rumana que se incorpore al sistema educativo vasco se le exima del conocimiento del castellano

en su casa viven solo en castellano o se piensa que todo el mundo habla castellano

bakarrik esango nizueke en función del entorno lingüístico esaten duzuenen

el alumnado matriculado en la educación secundaria obligatoria o en el bachillerato

vasca y literatura informará de la necesidad de esa exención y cita las circunstancias

por una parte su historial académico el del alumno o de la alumna o las características sociolingüísticas del entorno

ustedes dicen con el objetivo de mejorar el acercamiento al euskera bueno gutxi iruditzen bazaizue lau urte ematea

en primer lugar a la representante del partido nacionalista vasco cuando dice cosas como

hablan castellano bueno los datos que yo tengo son los de la misma consejería

en el veintisiete por ciento de las casas se tiene el euskera como lenguaje coloquial en el último informe del consejo escolar de euskadi ha bajado dos puntos

por qué sucede esto es que no lo entiendo resulta que ha bajado dos puntos y tienen ustedes el informe del consejo

veintiséis al veinticuatro las familias que en sus casas tienen como lenguaje vehicular el euskera

darle la vuelta a la situación y esto no mejora no estarán ustedes haciendo algo mal me pregunto yo desde luego yo no sé

es una sociedad plural pero yo cuando ustedes describen la generalidad de euskadi es que no la reconozco es que usted va por cantidad de sitios pero donde se concentra la mayor parte de la población

eso quiere decir que tenemos que hacerlo de otra forma al señor pastor le diré que me ha leído usted toda la intervención de isabel celaá porque yo la había leído también prácticamente palabra por palabra en algunos trozos

que se pueden hacer esas excepciones pero sabe lo que pasa que la aplicación de ese decreto se regula todos los años por una resolución de la consejera

y esa resolución no contempla ninguna de esas posibilidades que usted dice esa resolución es rompe y rasga entonces cuando usted me hacía algunas preguntas aquí nadie está hablando

claro que no pero estamos hablando de esos contadísimos casos

que son poquísimos para los que estamos pidiendo que no se evalúe en la última prueba

en los poquísimos casos a la señora rebeka ubera mire yo a los juicios de intenciones no respondo

deben de odiar al euskera esos son juicios de intenciones que usted se hace

de hacer política no lo hago pero sí que le voy a decir y esto no es juicio de intenciones que demuestra ser usted

con esas personas contadísimas para las que el mismo decreto ya reserva una posibilidad posibilidad que se cercena en la resolución o sea usted no me puede comparar las matemáticas con el euskera y la literatura tienen razón literatura y

de euskera no me lo puede comparar porque probablemente esa persona que ha venido de fuera

lo que es nuevo para esa persona es precisamente el euskera y el euskera no es una lengua fácil para hablar en euskera hay que pensar distinto sintácticamente se declina no se forma con preposiciones

es difícil entonces yo lo que les pido es que no

con esos cuatro cinco casos que puede haber cada año de personas que han venido a estar entre nosotros y creo

debemos primero enseñárselo nadie pide una excepcionalidad para la enseñanza pero para esa evaluación a esas cuatro cinco personas tomando como base el decreto porque ni tan siquiera estoy pidiendo

una nueva redacción porque eso existe en el decreto lo que estoy pidiendo es que le pidamos a la señora consejera que cuando hace sus resoluciones tenga en cuenta tres cuatro personas que tienen ese problema y que por favor en aplicación de ese decreto se lo resuelva y por lo último a podemos yo me alegro mucho que se haya explicado usted ahora pero la literalidad de su enmienda

está tan mal para acercar al euskera etcétera etcétera

bertatik señora bengoechea no hay lenguas difíciles eso es un mito

y solo voy a dar dos datos y termino en treinta años el porcentaje de vecinos de bilbao que sabe y conoce el euskera es el cincuenta y uno coma dos por ciento de la población total

por tanto las cosas no se han hecho tan mal eskerrik asko eskerrik asko mendizabal andrea